durante más de un año hemos definido su estructura y objetivos en un trabajo compartido tenemos claro que nos tenemos que aprovechar como sociedad de las fortalezas de las tres universidades que forman parte de nuestro sistema universitario vamos a coordinar sus esfuerzos y trabajar conjuntamente en la consecución de objetivos previamente definidos por el gobierno vasco trabajando en equipo pero con autonomía universitaria y con la corresponsabilidad de todas sus partes con la implicación de la

de hecho este plan pasa a denominarse plan del sistema universitario vasco a diferencia del plan universitario anterior

con este plan pretendemos impulsar una estrategia y unos objetivos comunes para todas las universidades con la colaboración también del conjunto del ecosistema universitario

euskampus mediante una política universitaria y de investigación

las relaciones universidad más empresa la formación basada en metodologías y métodos innovadores la internacionalización y la comunidad universitaria

ehuneko hamara hazi da pero sobre todo la fortaleza del plan está en sus cimientos

por las tres universidades con su rectora y rectores a la cabeza se han alineado absolutamente con el planteamiento realizado por parte del gobierno vasco

el sistema universitario vasco se va a enriquecer en su conjunto con este trabajo en equipo en beneficio de toda nuestra sociedad eskerrik asko uriarte

me gustaría remarcar ante esta cámara que desde el departamento de salud y osakidetza

todas las decisiones adoptadas por los tribunales y en este caso como no podía ser de otra manera respetamos también la decisión que el pasado trece de marzo adoptó el tribunal superior de justicia del país vasco dicho esto me gustaría añadir que se trata de una sentencia no firme

el recurso de casación autonómico planteado ante este mismo tribunal por lo tanto toca esperar y eso significa que por ahora
no debemos tomar ninguna decisión a este respecto eskerrik asko eskerrik asko murga

no es una sentencia firme y no es definitiva no podemos crear falsas expectativas entre los profesionales que no podamos cumplir posteriormente por lo tanto parece razonable intentar no sacar conclusiones precipitadas y esperar a ver qué se decide respecto al recurso de casación que sigue pendiente de resolución le aseguro

los tribunales auzitegiek

que en los últimos meses en este mismo ámbito se han dado sentencias muy diferentes entre sí aun así lo hemos dicho en más de una ocasión la voluntad de osakidetza ha sido en los últimos meses

la apertura del desarrollo profesional para este dos mil diecinueve así se lo planteamos a los sindicatos en la mesa sectorial del pasado diecinueve de febrero y de hecho en las próximas semanas osakidetza

ya a pagar el abono del complemento de carrera profesional desde enero

nuestra voluntad es clara nosotros también lamentamos que durante los años más duros de la crisis

junto al resto de la sociedad vasca sufriera las consecuencias económicas de esta el dinero de las arcas públicas

a mantener el conjunto del sistema sanitario público para poder atender las necesidades de todas las personas con un servicio sanitario de calidad y con equidad como así ha sido todos estos años esos tiempos

el momento de retomar ese complemento económico y es lo que estamos haciendo aurrera goaz beraz aurrera pasoak

a causa de la mala gestión de su gobierno del escándalo de las ope de osakidetza cómo valora usted la situación de su gobierno

señor lehendakari yo creo que su gobierno se describe por dos pilares fundamentales a día de hoy uno que está en minoría dos que acaba de tener usted que cambiar al responsable de una consejería clave a causa

escándalo creo que eso no es precisamente una situación saludable de hecho creo que precisamente necesita probablemente a un doctor

no hubiera estado de más algo de autocrítica por su parte

viendo la información publicada ayer por la tarde que el propio consejero

de mala gestión ahora entendemos mucho más y mucho mejor el absoluto respaldo que ha recibido el exconsejero

y sobreexagerada reacción de su partido el pnv

y que agradecerle haber aguantado todos estos meses cuando probablemente él entendió desde el primer momento que había una responsabilidad política

y sí que deploramos que usted lehendakari le haya usado como escudo

en soledad todos estos meses algo que a usted también le correspondía haber abordado

obligación de recordarle a usted y a su partido que lo que viene haciendo la oposición en los últimos meses

la tarea que tenemos de control al gobierno y de sacar las cuestiones que el gobierno no es capaz de gestionar porque ustedes además de no haber gestionado bien

de las ope lo que no gestionan bien ningún día de estos es la minoría y no asumen que están

cuál es el sentido de su gobierno señor lehendakari me pregunto yo después de denostar a la oposición durante todos estos días qué actitud va a tomar usted para gestionar sus objetivos con un gobierno en minoría y que prácticamente

afuera de cualquier espacio de diálogo ha roto fuentes con la oposición yo creo que tiene dos alternativa humildad ponerse el traje de faena

diálogo sincero con la oposición para que esta legislatura sea útil y podamos sacar las leyes que están abiertas con el máximo

demuestre su utilidad a una ciudadanía que está cada vez más harta de palabras vacías y que además ve

y luego la segunda parte sería que usted decidiera tomar el camino de la soberbia

y exigir responsabilidades ante la mala gestión y si se empeñan en tirar para adelante en solitario con una actitud victimista en vez de liderazgo desde luego que ese control será

pero tenga por seguro que no vamos a blanquear la poca capacidad del gobierno para negociar con la oposición si él responde a una real estrategia electoralista y a una estrategia

tenga por seguro de que estaremos a la altura de lo que necesita euskadi pero una vez más tengo que recordarle

que los intereses de euskadi no son los intereses del pnv

badituzue elkarrekin podemosen mahai gainean el gobierno se guía por el cumplimiento del programa este es el compromiso que mantenemos con la sociedad estamos dando respuesta a los pilares compromisos e iniciativas del programa de gobierno y también a los quince objetivos de país

diálogo y colaboración somos conscientes de ello estos objetivos tienen que ver con la reactivación económica y el empleo por lo tanto con la nueva ley de empleo público o la reforma de lanbide tienen que ver con la cohesión social y por lo tanto con la renta de garantía de ingresos o las ayudas a las familias tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres y por lo tanto con la nueva ley de igualdad y la radicación de la violencia machista contra las mujeres

aparque su reflexión sobre la situación del gobierno y aborde la situación del país hemos alcanzado acuerdos con ustedes acuerdos con los que hemos creído
que avanzamos son acuerdos que sirven de base para la disposición que tenemos también para con ustedes eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

seis meses preguntaba a su predecesor en el departamento de turismo comercio y consumo por las características del programa de ayudas al emprendizaje comercial

los últimos datos estadísticos que nos proporciona el instituto nacional de estadística indican que las ventas del comercio minorista en euskadi crecieron en enero

tres décimas más que en el conjunto de españa y que el empleo en este sector comercial experimentó un incremento del uno coma tres por ciento

que la media española euskadi en enero fue una de las nueve comunidades autónomas donde aumentaron las ventas en términos interanuales y aunque los números los datos son importantes más nos deben importar las personas que cada día con un esfuerzo personal levantan las persianas de sus negocios de sus comercios con alguna incertidumbre respecto al presente y al futuro más próximo en el sector comercial

la percepción que nos trasladan las federaciones y las asociaciones de comerciantes es que conseguir estos resultados positivos está siendo complicado y lo será aún más

y el ecosistema comercial vasco señalado como ejemplo de buena práctica desde otras comunidades necesita de personas emprendedoras y necesita también de herramientas que soporten que apoyen y que impulsen

nuevos modelos de compra están siendo adoptados de manera global en el mundo y en euskadi también aquí en euskadi el modelo vasco de comercio lleva tiempo en una encrucijada porque por un lado estamos siendo testigos del cierre de comercios tradicionales en nuestras ciudades y pueblos

existen nuevos modelos de negocio que surgen como resultado de la incorporación de nuevos actores al sector comercial porque están incorporándose a este sector

respecto a los negocios comerciales que esperan un impulso que esperan una ayuda desde las administraciones públicas para poner en marcha esas ideas de negocios ideas nuevas respecto al comercio personas que esperan de las instituciones acciones en el ámbito de la competitividad de la formación en gestión respecto a las nuevas tecnologías respecto a la dinamización comercial

el emprendimiento exige del gobierno vasco y de las instituciones públicas competentes un impulso importante de medidas y programas para relanzar el sector comercial y por eso los socialistas vascos queríamos saber consejera qué balance hace usted de ese programa

comercial como responsable máxima del departamento de turismo comercio y consumo que hace unos meses puso en marcha este programa de ayudas muchas gracias

egun on denoi efectivamente el comercio se está enfrentando a un cambio de modelo un modelo en el que reconversión y modernización sectorial

pero más robusto y sólido cualitativamente en términos de modernización rentabilidad y empleo por tanto actualmente vive

donde las políticas de emprendimiento y competitividad constituyen dos herramientas estratégicas de consolidación y modernización del sector y son un elemento clave para garantizar no solo el servicio comercial a la ciudadanía sino la calidad de vida y la cohesión social de nuestro modelo urbano por ello desde el departamento

el emprendimiento comercial para autónomos empresas y municipios una orden de ayudas destinadas

la empresarial y la institucional con un objetivo muy claro por un lado apuesta por la rehabilitación de zonas urbanas con preferencia para las más desfavorecidas con ayudas a la mejora en infraestructuras y servicios de las mismas

el emprendimiento y la creación de espacios en los que compartir conocimientos y experiencias construyendo así nuevas zonas destinadas a la actividad comercial de proximidad en una primera convocatoria se destinaron dos coma dos millónes de euros uno coma dos millónes para ayuntamientos

la mitad de este segundo importe se destinó a empresas comerciales lideradas por mujeres debido a la alta demanda y la necesidad de maximizar al tope el apoyo al sector

esta ampliación se centró exclusivamente en empresas y autónomos se han presentado veinticuatro solicitudes de ayuntamientos de los tres territorios históricos de las que se han estimado veinte con una inversión inducida además de uno coma cinco millónes de euros y un importe subvencionado de uno millón de euros

se han resuelto de manera estimatoria doscientos veintiuno solicitudes

y un importe subvencionado de uno coma ocho millónes de los cuales el cincuenta por ciento ha sido destinado a proyectos de mujeres como he comentado anteriormente en definitiva se trata de proyectos que buscan favorecer el emprendimiento comercial tanto para quien inicia la actividad

y para proyectos de actuación de los ayuntamientos en un contexto de innovación y singularidad comercial por ello este programa en este nuevo año seguirá enfocado a ayuntamientos y emprendedores que respondan a estos criterios

de favorecer la evolución de los espacios y los entornos urbanos de forma que se generen los ecosistemas necesarios para el desarrollo de la actividad comercial en particular
y de la economía urbana en general eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta muy buenos días señor lehendakari la verdad es que la realidad me contestó la pregunta desde que la registré la semana pasada su gobierno no es que esté en crisis

crisis y yo le diré por qué pienso que las cosas han ido así tienen ustedes mucho poder pero su gobierno es débil realizan ustedes un marketing con cierta habilitad pero claro su marketing está enfocado exclusivamente

y a ocultar los errores y deficiencias de su gestión el problema es que cuando se tiene tanto poder y ustedes piensan que han tenido tan absoluto éxito en la gestión de la política de las cosas o en lo de los votos

y en esa situación se decide que es mejor no tomar ninguna decisión

de rumbo vamos a examinar la gestión política que ha hecho usted en los últimos tiempos cuando empezó la legislatura aquello parecía una cosa prometedora tenía usted un acuerdo de gobierno y tenía también

decidió prescindir de los apoyos decidió liquidar la relación con el partido popular cargarse al señor rajoy en fin cambiar todas las cosas ya hoy es

elecciones y pensó que si le firmaba un papelito soberanista a los de bildu

para construir distopías pero para las cosas prácticas no sirven porque no le han aprobado a usted los presupuestos y porque

y yo creo que en esa falta de definición política esa falta de objetivos ese miedo a perder el poder si se inclina hacia un lado o se inclina hacia otro lado esa búsqueda permanente de una especie de centralidad que consiste en la nada pues la gestión sufre y la gestión los resultados son los que sufren dice usted yo cumplo mi programa pero los resultados son malos

no sabe ni comprar coches y cuál es la respuesta que nos da que ha subido el turismo

el año pasado se creó empleo empleo público se destruyó empleo privado

en la margen izquierda tiene una tasa de paro del veinte por ciento dónde están sus planes sus proyectos sus medidas dónde están las decisiones que puedan orientar con claridad el modelo educativo sufre

podría seguir repasando las acciones de su gobierno su consejera dónde está su propuesta de modelo de protección social que realmente cambie y dé solución a los problemas que día a día denuncian los vascos

sus consejeros están en una situación de debilidad porque usted no ejerce su liderazgo en la gestión política de este gobierno

esa reflexión y que debería pensarlo porque queda año y medio para que termine la legislatura y sinceramente no sé cuál va a ser su balance ha aprobado usted cuatro proyectos de ley

claro yo le tengo que decir estas cosas porque a usted que todo el mundo le quiere tanto

todo es una loa todo el mundo le hace la pelota tiene mucho poder una situación muy consolidada todo el mundo habla bien de usted y todo el mundo le hace la pelota pero la realidad es que el gobierno hace aguas que el pagano ha sido un buen consejero que es el señor darpón

cada quince días que usted viene reproduciendo pleno de control tras pleno de control usted sabe que la realidad es otra muy diferente a la que usted ha pretendido dibujar hoy usted lo sabe y usted sabe también de las

algunas de las cuestiones que usted ha planteado hoy aquí como déficit del gobierno cuando son déficit de los propios grupos parlamentarios de la oposición en todo caso

y la novedad le diré no está en el gobierno la novedad no está en el gobierno está en la oposición en la manera de hacer oposición

euskal herria bildu y elkarrekin podemos suman sus votos

al gobierno cuánto han cambiado las cosas en estos tres meses desde que ustedes rechazaron el proyecto de presupuestos del gobierno vasco para este año cuánto mire no hemos hecho crisis y no hay ninguna crisis porque el gobierno mantiene la misma fórmula que al inicio de la legislatura

y los resultados están a la vista de todas y de todos

ostensible cuando el partido popular eh bildu

suman sus votos en la estrategia política de desgaste al gobierno para eso sí sirve eh bildu verdad señor alonso para eso sí sirve

euskal herria bildu y elkarrekin podemos en sus socios estratégicos en la manera de hacer oposición es su decisión respetable aunque choca que el partido político que históricamente ha representado

según sus propias palabras decida sumarse a la manera de hacer oposición de la extrema izquierda revolucionaria vasca según sus propias palabras

en lugar de convertir proponer o hacer se une para criticar para cuestionar y para deshacer para deshacer proyectos para deshacer propuestas y trayectorias a veces también con un gran coste personal señor alonso pueden hacerlo

es su decisión a partir de aquí lo único que le puedo decir es que el gobierno va a seguir trabajando

de nuestro programa la agenda institucional del gobierno trabaja para que euskadi siga siendo referencia también en políticas de salud en educación o en bienestar social en ese bienestar social para lo cual es necesario también la reforma de la renta de garantía de ingresos cuyo debate usted me pidió que lo pospusiéramos señor alonso

para seguir creciendo y situar el paro por debajo del diez por ciento para ser pioneros en el compromiso contra el cambio climático

del partido popular no es el gobierno pero como bien sabe la disposición y voluntad dialogar para construir acuerdos tal y como hemos demostrado con ustedes con euskal herria bildu y también con elkarrekin podemos beraz eusko jaurlaritzak

lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días bien venezuela ya llevan muchos años en ese país ya llevan mucho tiempo

política económica social humanitaria ese país tan estrechamente ligado a nosotros

una dictadura machaca permanentemente a muchas personas

o de origen vasco descendientes de vascos

señor lehendakari hablamos de ello en el parlamento vasco y aprobamos una proposición no de ley exigente y de referencia con la situación que vive aquel país usted no pudo asistir a aquella sesión plenaria en aquel momento

oír su opinión sobre lo sucedido sobre todo cuando afecta a personas vascas que sufren la crisis

en el país vasco en euskadi en españa para poder tener alguna esperanza ese es el elemento fundamental y lo que nosotros le queremos oír hablar y referirse en esta sesión usted el año pasado

a las personas que fueron a venezuela y también a esas duras condiciones en las que viven muchos

o qué está haciendo y qué podemos hacer todos los vascos para ayudar

que sufren ese azote de la crisis social política humanitaria como decía antes quiero recordarle

en ese pleno en el que usted no estuvo en parte se aprobó la siguiente enmienda de transacción a una proposición no de ley sobre la situación

recordaba además los pronunciamientos de instituciones de la unión europea

y apoya a la asamblea nacional como una institución democráticamente elegida

cómo la situación la dictadura machaca también esa situación

a dónde llega también decía la iniciativa que el parlamento vasco exige que los derechos civiles la libertad y seguridad sean respetados aplicados al conjunto de la ciudadanía pero en especial a todos los miembros de la asamblea bueno hacíamos esa reflexión

el parlamento vasco apoya a juan guaidó presidente de la asamblea nacional

auspiciadas por la onu y otros observadores internacionales nos referíamos a eso ya más concretamente también hablábamos desde el parlamento vasco

y a los diferentes cuerpos policiales al respeto a los derechos humanos nos preocupábamos de eso también desde luego muy importante que se asegure la integridad y la seguridad de todas las personas

y hablábamos también de que el parlamento vasco reitera su profunda preocupación ante la crisis social que sufre

venezuela y exige que toda la ayuda humanitaria sea urgentemente trasladada a la población para aliviar las crueles privaciones que sufren diariamente eso entronca también con esa cuestión por la que nosotros

y por eso mismo sirva esta interpelación para conocer esa visión suya de su gobierno sobre la situación allá en venezuela y qué podemos hacer

también fue debatida otra distinta en dos mil diecisiete hemos visto más

tuvimos la oportunidad de recibir en la comisión de asuntos europeos y acción exterior

también tuvo la oportunidad de hablarnos de la situación ya también a finales de dos mil diecisiete o sea que en ese sentido estamos preocupados y queremos seguir

por eso le decía que sirva esta interpelación para conocer su visión sobre la situación de venezuela y sobre qué podemos hacer desde aquí para apoyarles y para facilitar aliviar su situación incluso facilitar el retorno

de su departamento tanto las materias que tienen que ver con cooperación

responsabilidad tienen un papel que jugar en esta grave situación que se vive allá y que sufren muchas personas personas vuelvo a decir también

de vascos está claro que el análisis que usted puede hacer por su conocimiento de la situación precisamente porque su departamento alberga todas estas responsabilidades que le he dicho antes

esta interpelación desde luego fue consecuencia también de lo que fue el debate de esa proposición no de ley fue presentada el cuatro de marzo hemos visto que el día doce de marzo tenía que haber sido sustanciada el ocho de marzo

no se pudo celebrar este pleno y no se sustanció pero hemos visto que el gobierno

desde luego ahora en relación con lo que vimos anunciado el pasado día doce en el consejo de gobierno

forma parte de un primer paso de algo que seguramente tiene que ser más amplio

lo que nos anuncia esas ayudas de extrema necesidad son desde luego necesarias y esperemos que se enmarquen en lo que debe ser un plan de actuación más completo

eventuales pero también estructurales que estamos viendo y que nos transmiten también las personas que desde venezuela nos cuentan cómo están viviendo y qué necesidades tienen

y ayudar a los vascos que en venezuela hoy lo pasan mal tenemos que hacerlo desde euskadi apoyar ayudar a esos vascos a esas vascas que los pasan mal

lo hemos hecho políticamente hemos apoyado y hemos aprobado una declaración de referencia en relación con lo que está sucediendo con esa crisis social política económica humanitaria pero también apoyando la proposición no de ley tenemos que pasar y dar un paso más

a la que la dictadura ha llevado a un pueblo tenemos que dar más pasos decididos a la hora de ayudarles a enfocar su futuro incluso ese futuro pasa por el

por otro tipo de ayudas por cómo enfocar muchas de esas personas que tuvieron su origen aquí una nueva vida un nuevo futuro pero también

diario deia en relación con los refugiados venezolanos un amplio reportaje

hablaba de que desde dos mil dieciséis el número de personas llegadas de venezuela que se han establecido en euskadi se ha multiplicado eso ya era el año pasado antes de toda esta expresión última política que está viviendo ese país y por eso y en ese sentido yo creo que es bueno a la vista de esas circunstancias de la circunstancia que viven vascos y vascas en venezuela a la vista de los pasos
que ha ido dando este parlamento a la vista de las necesidades que se nos transmiten todos los días isiltasuna mesedez gracias presidenta queremos saber

de apoyar a las personas vascas que viven en venezuela o que tienen sus intereses comerciales laborales etcétera en aquel país ante la grave crisis política y social que padecen muchas gracias

en su intervención un pleno en el que como usted bien ha dicho en parte no estuve en parte sí estuve en la parte en la que no estuve es porque estuve en el tribunal supremo prestando declaración la crisis que sufre venezuela se prolonga desde hace más de lustro

de hecho venezuela se ha convertido en un referente de la política internacional la causa es que la crisis interna político institucional

además esta crisis ha adquirido una dimensión regional por la salida según algunas estimaciones de entre tres y cuatro millónes de personas emigrantes y también una dimensión internacional vista la participación activa de estados unidos china además de la unión europea que define nuestra posición ante esta realidad desde un punto de vista institucional y político el gobierno suscribe plenamente la proposición aprobada en el parlamento y en su día también hicimos una propia declaración del gobierno

pertinente del consejo de gobierno tenemos muy presente que venezuela ha sido país de acogida para las y los vascos usted ha hecho referencia a ello

de la salida de cientos de familias vascas hacía este país como consecuencia de la guerra civil y la dictadura en aquel momento un convenio entre el gobierno de euskadi en paris

que aceptaban las condiciones negociadas gracias a aquel convenio el gobierno venezolano

comprometiéndose las familias vascas a reintegrar el montante de esos gastos en un tiempo prudencial aquel proceso no estuvo exento de dificultades pero se configuró

y emprender nuevos proyectos vitales desde cero reiteramos por lo tanto todos los puntos aprobados en la proposición desde el primero que se suma a la solicitud de la unión europea de que se celebren a la mayor brevedad

en venezuela hasta el último punto pasando por el cuarto punto que usted también ha mencionado

dicho lo cual en respuesta a su interpelación señor barrio me voy a centrar en el punto quinto de la proposición dado que hace referencia a las privaciones

daré cuenta de las gestiones y actuaciones que viene desarrollando el gobierno vasco en relación a esta materia hoy en día efectivamente existen familias vascas residiendo en el país y el gobierno ha tratado y trata de mantener una estrecha relación con esta colectividad de la aprobación de la ley ocho barra mil novecientos noventa y cuatro de veintisiete de mayo de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior esta relación se ha ido consolidando en la actualidad mantenemos comunicación directa tanto con la federación de entidades vascas de venezuela

esta relación hace referencia que desde el gobierno vasco tenemos contacto prácticamente diario con estas comunidades y estamos al corriente de la situación que se está viviendo en el país

lo seguimos muy de cerca paralelamente a lo indicado usted señor barrio sabe que como también ha mencionado la secretaría general de acción exterior del gobierno cuenta con unas líneas de ayuda para la comunidad vasca residente en el exterior

establece el objetivo de posibilitar en el marco del ordenamiento jurídico y de las disponibilidades presupuestarias la ayuda asistencia y protección a las personas vascas fuera de la comunidad autónoma vasca asimismo la ley en su artículo ocho define las prestaciones a favor de los centros vascos contribuyendo entre otros objetivos

y en particular las situaciones de extrema necesidad de sus socios así desde el año dos mil tres y mediante decreto se viene convocando esta línea de ayudas este año dos mil diecinueve la convocatoria se encuentra abierta hasta el veintiséis de abril

en la pasada convocatoria a través de este mismo decreto se ayudó a ciento nueve familias de cinco países diferentes venezuela argentina chile cuba y méxico la media de ayuda por familia

todas y cada una de las solicitudes provenientes de venezuela este año se ha incidido y comunicado especialmente la convocatoria de estas ayudas a las comunidades vascas en venezuela así como también las organizaciones de ayuda a venezuela que trabajan desde euskadi lo hicimos

del doce de marzo que usted ha mencionado también creemos que esta línea

nuestro objetivo es poder atender el mayor número de familias posibles

y de forma complementaria hemos explorado distintas vías alternativas de actuación mantenemos contacto con organizaciones no gubernamentales

hemos explorado posibles vías de colaboración pero no han dado todavía sus frutos o el fruto deseado la realidad es que nicolás maduro

y como es conocido tampoco acepta la entrada de ayuda humanitaria

adicional porque la inestabilidad del país no permite hacer transacciones económicas directas con las garantías suficientes de forma adicional la agencia de cooperación internacional del gobierno vasco también está actuando así el pasado dos mil dieciocho concedió una subvención de ciento cuarenta y uno mil euros a la fundación alboan para que a través de su entidad colaboradora local y alegría venezuela contribuyera a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de un colectivo de más de seiscientos niñas niños adolescentes y jóvenes que cursan estudios en cuatro escuelas en los estados de apure y táchira

este proyecto se inició en septiembre del pasado año y se encuentra vigente dado que tiene una duración de doce meses en esta misma línea

a través de proyectos y estrategias de acción humanitaria de convocatoria pública con una inversión total de dos millónes quinientos mil euros en un inicio iniciativas estaban dirigidas a acompañar a la población desplazada en el territorio colombiano y a quienes buscaban refugio en venezuela o ecuador muchas de las actividades implementadas en venezuela involucraban a la población local que acogía a personas refugiadas colombianas

para responder a las necesidades de la población venezolana hacia colombia la intervención de este proyecto se orienta a desarrollar programas para la protección de personas en situación de desplazamiento y refugio

así como el fortalecimiento de las capacidades personales para la integración social son ejemplos señor barrio

tanto estructural como coyuntural del gobierno vasco que como digo mantiene todos los cauces de relación atención y ayuda a venezuela abiertos

gracias presidenta gracias lehendakari por las respuestas efectivamente somos conocedores también

puntuales o un tanto más instaladas en el tiempo o de carácter general es decir sí nosotros también

venezolanos y venezolanas vascos y vascas que nos cuentan y que nos dicen cómo está la situación también efectivamente

ejemplar en venezuela en ese sentido entendemos que

hay que hacer y desde luego exigir a un gobierno como el suyo que tiene potencia en lo que es

de defensa de los derechos humanos nosotros hemos colaborado también como parlamento en esa cuestión en otros países y en otros programas yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión puntual sobre venezuela

que reconociendo además que esas gestiones ese contacto diario que usted ha dicho esas ayudas o esos pasos esas actuaciones algunas fructíferas otras infructuosas por culpa

o sea yo creo que trataremos al ser esto una interpelación y vuelvo a decir en un sentido constructivo de hacer una reflexión a través de una moción

de origen vasco de ascendencia los venezolanos vascos de allá

un tanto más asentada o estructural viendo que la crisis se lleva prolongando mucho y que se sigue prolongando es

en otras comunidades autónomas algunas estrategias en relación con cuestiones que

abordarse específicamente bien dentro de un marco general del retorno pero también ampliando con otro tipo de ayudas hemos visto estrategias en comunidades autónomas como la xunta de galicia que ha fijado una serie de

son referencias efectivamente allá tendrán que hacerlo de una manera nosotros tendremos que hacerlo de otra las cuantificaciones de las personas

sí que traeremos quiero decirle que lo haremos de una manera constructiva y a los grupos parlamentarios también pues para buscar a través de una moción qué pasos más dar elemento qué plan de actuación de una manera estratégica y concreta podemos dar en relación con la situación que viven estas personas

comprometido a analizarlo y yo creo que será bueno que desde este parlamento de la misma manera que lo hacemos

y analizar un plan de actuación conjunto y comprometido en relación con aspectos tan importantes como el retorno yo creo que ese elemento es así nosotros

de este planteamiento en relación con hacer un planteamiento estructural buscar una fórmula en esta cámara

andrea señor barrio en la primera intervención he hecho mención también a cuáles fueron por ejemplo las circunstancias que se dieron en cuanto a la acogida al exilio vasco en venezuela y las condiciones que se dieron también para

se alcanzaron entre el estado español del momento o en su caso el estado venezolano que era el que tenía la capacidad de

en todo caso en la primera intervención me he centrado especialmente en las actuaciones que desarrollamos en venezuela ahora bien reitero que mantenemos un permanente contacto con las entidades y asociaciones que trabajan desde euskadi a favor de venezuela

hemos mantenido reuniones con el colectivo de personas pensionistas venezolanas residentes en euskadi nos han trasladado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas residentes en el exterior como consecuencia del impago prolongado de sus pensiones por parte del ejecutivo venezolano

como gobierno vasco hemos arbitrado una solución de forma que a efectos del cálculo de la renta de garantía de ingresos en euskadi se tengan en cuenta los ingresos reales percibidos y no los teóricos estamos hablando por ejemplo de la situación de las personas pensionistas venezolanas residentes en euskadi una vez más quiero

del pueblo vasco euskadi siempre ha sabido responder y atender a las necesidades de otros pueblos y hoy también estamos respondiendo a venezuela mediante distintas iniciativas cabe destacar por ejemplo la iniciativa de la asociación de colombianos en euskadi pueblo hermano de venezuela que con apoyo institucional

que pretenden emprender un nuevo proyecto vital lejos de su tierra la secretaría general de acción exterior atiende las consultas de personas venezolanas que quieren volver a venir o venir a euskadi en busca de un futuro mejor

pero como puede comprobar señor barrio el gobierno vasco se ha mantenido informado y en contacto tanto con la comunidad vasca en venezuela como con la comunidad venezolana

mantenemos las líneas de ayuda y estamos arbitrando nuevas iniciativas adaptadas a la gravedad de las situaciones que se están produciendo no es una cuestión fácil

pero con realismo y desde la capacidad que el ordenamiento jurídico nos posibilita y en la medida de nuestras posibilidades y recursos

ante las dificultades existentes y la evidencia de que estas dificultades siguen creciendo por lo tanto señor barrio el gobierno vasco va a seguir trabajando analizando las posibilidades legales e incluso en relación a esa medida que usted plantea cuestión que como he dicho antes

de manera permanente dentro de lo que son las capacidades que el ordenamiento jurídico nos confiere

y en las que por lo tanto también el estado español tiene qué decir en todo caso vamos a seguir trabajando y prestando toda la colaboración que sea posible

es que no hay manera de que españa se democratice

se encogen de hombros y les permiten continuar con la apología

y pretenden hacernos pasar por hechos anecdóticos lo que en realidad son síntomas gravísimos de un estado profundamente regresivo y antidemocrático

veintiseis mil euros de deuda por habitante

a los contribuyentes con lo cual si nos preguntan qué pone en tu dni

por ser españoles que además no queremos ser algo que

los abogados del estado las abogadas del estado y los magistrados franquistas luzcan sus medallas

de unas dotes en todo caso no sé si adivinatorias pero sorprendentes yo creo que usted

y de involución para nuestro país según lo que reza en la justificación de su interpelación a mí

escuchar primero la voz del pueblo y avanzar a continuación las líneas de actuación en todo caso

a abordar cualquier escenario futuro y comparto con usted los principios de actuación que trataré de hacer valer como lehendakari primero un principio ético y de convivencia defenderé una memoria critica que reconozca la injusticia del daño causado ante cada uno de las vulneraciones de derecho humanos provocadas en el pasado

y promover una convivencia conciliada es un compromiso irrenunciable de presente y de futuro segundo un principio de solidaridad progreso y cohesión social

de progreso social la protección y ayuda a las personas que más lo necesitan conforma una prioridad de nuestro gobierno tercero un principio de actuación por prioridades

gobernando con el cuadro de prioridades para responder a los cuatro retos de país además de los objetivos de país y de su propio programa de gobierno educación reto demográfico y juventud

un principio de actuación basado en la anticipación de escenarios nuestro escenario va a ser un mundo cada vez más global abierto y competitivo somos un país pequeño y necesitamos una hoja de ruta

responder a los cambios tecnológicos y económicos cambios en salud educación energía movilidad o medio ambiente quinto un principio de defensa del autogobierno la convivencia basada en el respeto a la singularidad de nuestro autogobierno y el pluralismo de la sociedad es principio básico

vamos a defender el autogobierno reconocido como un legado irrenunciable vamos a trabajar por el cumplimiento íntegro del estatuto y la transferencia de todas las competencias pendientes

para un nuevo estatus desde el acuerdo no desde la unilateralidad mire

desde el acuerdo usted menciona querer irse y que es urgente es además irse mire yo creo que el ejemplo lo tiene en el brexit

ha votado la salida pero tienen que renegociar las condiciones de esa salida

y plantean la posibilidad de un segundo referéndum no es tan fácil señora iriarte como ir a méxico y decir independencia o decir seremos una república

interdependencia y siempre será necesario acordar

la vía unilateral que ustedes dicen defender no es tal siempre hay que negociar y acordar e incluso la salida

negociando y acordando no será mejor hacerlo desde el principio etorkizunaz ari garela zer egingo den esateaz gain garrantzitsua da

behar dugu las elecciones generales modificarán sí la actual representación parlamentaria pero las elecciones no resolverán por sí los grandes problemas pendientes tras el veintiocho de abril seguirá siendo necesaria una coincidencia mayoritaria favorecedora

y le aseguro que seguiré propiciando esta vía con firmeza con constancia paciencia y determinación es la vía de la construcción nacional

usted ha dicho que euskadi euskal herria es más que la comunidad autónoma lo dice en su justificación de acuerdo hoy precisamente tras este pleno acudo a la asamblea de la euroregión en iruña

avanzar en un proceso de relación e integración institucional pensando en el futuro de europa

reclamamos la institucionalización de las regiones con capacidad legislativa y vamos a avanzar en esa vía nuestro futuro es la europa construida desde la suma de su pluralidad

exige cada vez mayores sacrificios eta

solo cuando se dan condiciones favorables solo cuando sirve para ganar ahora bien cuando las condiciones son desfavorables esta estrategia parece que ya no sirve y hay que cambiarla por una estrategia de imposición y la pregunta es cómo

su idea sin lograr acuerdos su alternativa en realidad es inviable sin lograr acuerdos no solamente entre nosotros sino sin lograr acuerdos también en el estado español

y la que ha seguido la mayoría de esta sociedad desde la transición hasta hoy euskadi

y muy desfavorables la apuesta estratégica del gobierno vasco ha sido la construcción progresiva desde el diálogo desde la negociación y desde el acuerdo y creo que

a una estrategia basada en la moderación la firmeza en los principios y la determinación y no hablo de castillos en el aire hablo de lo construido hablo de lo realizado hablo de la institucionalización del país que hemos construido y hablo de una institucionalización que está mirando al estado pero que mira también a la unión europea en los próximos cuarenta años esta estrategia seguirá dando frutos en coyunturas más o menos desfavorables

la activista la joven de quince años greta thunberg que en la pasada cumbre del clima de polonia en diciembre pasado

del mundo sobre el tema del cambio climático dijo una frase que va a resumir de alguna manera mi interpelación de hoy dijo no podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis y la realidad es que estamos ante una crisis

una crisis global y a nuestro grupo le importa y a mí personalmente nos importa qué respuesta dan los líderes del mundo ante esta crisis y usted de alguna manera es un líder es el líder de este país por eso le escuché con mucha atención en la pasada conferencia change the change que tuvo lugar en marzo qué decía

usted dijo que hay que cambiar la tendencia del cambio climático que es una urgencia usted dijo que en euskadi queremos ser avanzadilla que actuamos con hechos que tenemos un compromiso compartido y urgente y dijo también que es nuestro deseo legar a las nuevas generaciones un futuro mejor

y sin embargo los hechos de esta legislatura no van con esas palabras

el empleo tiene que ser uno de los objetivos el objetivo usted lo ha convertido en el objetivo de esta legislatura la pregunta es por qué no ha ligado empleo y futuro por qué no hemos ligado empleo y cambio climático lucha contra el cambio climático usted no estaba ya en la conferencia del pasado seis de marzo cuando

dijo que la actuación contra el cambio climático va a generar sesenta y cinco millónes de empleos en el mundo y la pregunta es dónde los va a crear se van a crear aquí en euskadi

dónde se van a crear y dónde se van a perder empleos entonces tenemos una necesidad de dar una respuesta urgente a esta cuestión

se juntaron seiscientos personas expertas la mayoría del mundo científico que lo que vinieron a revelar es

impotencia por la gravedad de los datos que ya se conocen impotencia por la indolencia de los gobiernos y por la lentitud con la que se están implantando los cambios

su gobierno y usted mismo no son negacionistas como otros líderes mundiales lógicamente pero frente al negacionismo se está imponiendo en el mundo político

sin negar el cambio climático que obviamente ya es una realidad científica e incontrovertida lo que propugnan es

que sean otros quienes den los pasos primero que nada cambie y claro en esta cuestión el principal problema que tenemos es

la propia vicepresidenta del panel internacional contra el cambio climático

su informe sobre el estado real del cambio climático vino a decir algo así como los años que nos quedan desde aquí hasta dos mil treinta doce años

los más importantes de la historia doce años eso es lo que nos queda

ekonomian eta gure bizimoduetan tenemos dos o tres legislaturas para

económicas y administrativas que necesitamos para ponerlas en marcha y para hacerlas cumplir y eso va a implicar necesariamente vencer resistencias

a nivel empresarial eso va a requerir pedagogía concienciación sensibilización y aquí en euskadi lo que tenemos ahora mismo es un círculo vicioso de

ausencia de liderazgo político en materia de cambio climático falta de concienciación y de sensibilización y

erantzukizuna eta erantzunak de este círculo vicioso en euskadi solo podemos salir con liderazgo institucional con liderazgo político

no voy a decir de quién es el problema pero en euskadi cuando se pregunta a la ciudadanía sobre cuán importante es el problema del cambio climático a nivel mundial tenemos

doce por ciento de personas que dicen que es un problema de primer orden a nivel mundial

un uno por ciento estamos con la conciencia de que aquí no va a pasar nada de que aquí no va a pasar nada y es un error es un error y es un error sobre todo porque como dijo greta thunberg

ella dijo ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo y esto me apela también a mí pero les están robando su futuro ante sus propios ojos y hemos venido aquí

les guste o no y eso también me interpela a mí greta thunberg nos interpela a todos los integrantes de esta cámara

escenarios posibles a nivel social a nivel económico

en euskadi también en euskadi el riesgo de olas de calor respecto al siglo veinte se va incrementar en un siete o un doce por ciento el riesgo de inundaciones

el riesgo de subida del mar se incrementa un veinte por ciento para los cincuenta y ocho municipios costeros

publicados recientemente en enero de este año por el departamento de medio ambiente nik ez dakit zuk ala arriola jaunak

eta lidergoa los jóvenes quieren respuestas

política en general de todos los grupos que estamos en esta cámara no le voy a adjudicar en exclusiva esa responsabilidad y como he dicho tenemos que tener en cuenta que nos quedan dos legislaturas y tenemos que convertir la necesidad

aborde un proceso de información sensibilización y participación como no se ha hecho antes social y empresarial que ayude a enriquecer el anteproyecto no presentado de cambio climático de manera que

contra el cambio climático que seamos capaces de usar nuestras competencias y nuestro autogobierno para diseñar las herramientas jurídicas y fiscales que necesitamos y que seamos capaces de poner en marcha nuestro entramado institucional para diseñar aquellas políticas de país

que necesitamos para adaptar nuestra economía para descarbonizar nuestra sociedad y para cumplir los objetivos de parís premiazkoa da zeozer

le contesto yo no soy negacionista ni tampoco dejo pasar las cosas sin más y le contesto yo porque

también como lehendakari asumido incluso y reflejado en lo que fue la presidencia de los entes subestatales a nivel internacional

que ostentamos con euskadi con australia sur y con quebec

organizado por el gobierno vasco señor becerra cómo no vamos a tener preocupación si hemos organizado nosotros o coorganizado

y dicha conferencia es el marco en el que hemos podido constatar que los efectos del cambio climático tienen un alcance mundial y nos ha permitido también contrastar que las políticas que estamos desarrollando en euskadi o con las que desarrollan los países más avanzados del mundo nos ha permitido también esa oportunidad o esa posibilidad

de alto interés político académico y social porque compartimos el mismo objetivo contribuir a cambiar la tendencia del cambio lo compartimos desde el gobierno vasco somos conscientes de que euskadi es un país pequeño con un peso muy reducido en las emisiones globales y podría refugiarme yo ante lo que son los riesgos que usted ha mencionado también de los estudios publicados por el propio gobierno vasco en el mes de enero en la excusa de que es un fenómeno global y que

todos y todas somos responsables efectivamente y es por eso que aun siendo un país pequeño con un peso muy reducido en las emisiones globales hace tiempo que tomamos conciencia del problema del calentamiento global y que comenzamos a adoptar medidas para su solución y buena prueba de ello es la estrategia vasca de cambio climático klima dos mil cincuenta

medidas de carácter integral y transversal el compromiso de euskadi ha quedado acreditado en esta conferencia internacional y con la celebración también de la semana vasca del cambio climático con acciones de todo tipo a lo largo de todo el territorio vasco quiero recordar también que nuestro gobierno prioriza quince objetivos de país evidentemente

de empleo pero eso no obsta para que hayamos fijado quince objetivos de país además de cuatro retos de país y priorizando quince objetivos de país uno de ellos es precisamente la reducción de un veinte por ciento en la emisión de gases de efectos invernadero para el próximo año para el año dos mil veinte

avanzar en el camino hacia la neutralidad en carbono esto es reducir las emisiones a la cantidad que pueda ser reabsorbida y a su vez proponer actuaciones para aumentar la resiliencia del territorio de hecho asumimos como propio el objetivo de que la economía vasca

el compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático crece en euskadi de abajo arriba y lo hace desde la base de la acción municipal contamos con una estrategia territorial y local

la red vasca de municipios sostenibles que cuenta con setenta y cinco municipios realizando inventarios de emisiones

de mitigación y adaptación al cambio climático sabemos que más aportación local significa más sostenibilidad global beraz becerra jauna euskadik

la lucha contra el cambio climático lleva años desarrollándose en este país y aunque para algunas personas pueda parecer que nunca nada es suficiente le invito en todo caso a usted que me hace esta interpelación a reconocer el avance porque le puedo asegurar que no me cuesta nada reconocer que tenemos mucho camino por recorrer

perfil del cambio climático en euskadi publicado este mismo mes presenta un panel de cincuenta indicadores clave para evaluar y mejorar nuestras políticas de lucha contra el cambio climático

muestra un grado de avance del cuarenta y cinco por ciento en su implementación en los dos primeros años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho

el cien por ciento de las actuaciones antes del año dos mil veinte

que incluye el objetivo de reducir las emisiones de ce o dos que estamos avanzando y que este es como le he dicho antes uno de los quince objetivos de país comprometidos por este gobierno

esta estrategia energética vasca y adecuarla a los nuevos objetivos explicitados por la unión europea en su paquete de invierno del pasado año pero creo que no partimos de cero y creo que también es necesario reconocer

un papel fundamental en la consecución de los objetivos climáticos que hemos realizado el diagnóstico de la economía circular y que hemos establecido los indicadores de evaluación que nos va a llevar a disponer de una estrategia vasca de economía circular en los próximos meses creo también que no partimos de cero

el pasado mes aprobamos la primera ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas en este parlamento a la que usted ha hecho referencia también con su voto

esta legislatura la ley vasca de cambio climático aunque todavía no se haya presentado pero que están en marcha esos trabajos no partimos de cero

alinea las políticas del programa de gobierno y las políticas sectoriales con las metas vinculadas a los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible

de la acción por el clima creo que se puede decir también que no partimos de cero si reconocemos que las nuevas directrices de ordenación del territorio a punto de ser aprobadas incorporan la perspectiva climática que lo hacen para anticipar desde la planificación territorios y urbana los cambios derivados del cambio climático

minimizar sus efectos sobre la salud sobre la seguridad de las personas sobre la agricultura o sobre el agua y también de prever los impactos sobre el transporte y la movilidad sostenible priorizando la proximidad y la accesibilidad por lo tanto creo que no hemos de negar la evidencia que las energías renovables crecen en euskadi pero que reconocemos que todavía tenemos que avanzar que las emisiones se reducen en euskadi y aun así reconocemos

que la conciencia social se extiende en euskadi pero que efectivamente reconocemos que tenemos que profundizar más en este extremo por lo tanto señor becerra

seguir avanzando porque avanzamos y lo vamos a hacer desde la corresponsabilidad pero también con la ambición y con la urgencia que nos demanda la sociedad y especialmente como usted ha hecho mención en varias ocasiones en su intervención

la juventud y en este sentido creo que es importante también en el día de hoy reconocer las proposiciones no de ley aprobadas en las semanas pasadas

quien me conteste y tengo que decir que yo no le considero

he contrapuesto el concepto de negacionismo con el retrasismo el retrasismo es de quien

que hagan otros que otros se muevan y luego ya veremos me parece muy interesante

que el principal objetivo del país sea la reactivación económica es una cuestión que compartimos

con el futuro que supone la transición ecológica la transición energética la lucha contra el cambio climático por qué no hacemos

retrasista permítame la palabra porque la palabra no existe

en otros sitios esto a nivel estatal se ha visto claramente con las energías renovables fue

y empezaron a hacer aerogeneradores y empezaron a hacer placas solares en otros sitios

nos quedamos con la mitad del negocio que teníamos por lo tanto yo claro que le voy a reconocer que el gobierno algo está haciendo

que lo que nos está diciendo el mundo científico es que vamos tarde que vamos tarde que vamos retrasados que no podemos ir al trantrán

no hay futuro y por eso le apelo

las bases usted me ha dicho que tenemos en euskadi la estrategia vasca

se hizo ya en julio de dos mil quince ya tiene tiempo los objetivos están desfasados tenía que haber tenido un informe de seguimiento en dos mil diecisiete que lo hemos pedido no está hecho

sobre las emisiones reales de la economía vasca es decir

reconózcame que están haciendo poco y entonces llegaremos a un acuerdo y veremos cómo podemos solucionar la cuestión ha mencionado usted y ha dicho bien

tremendo que un gobierno como el gobierno vasco no tuviera dinero para organizar en exclusiva la conferencia y que tuviera que cederle

el protagonismo a iberdrola porque puso el dinero y tuviera que cederle el protagonismo al señor sánchez galán que no tenía nada que decir

para que diera su discurso vacío de siempre

que nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero la conferencia change the change fue un ejemplo de eso la patrocinaba iberdrola la patrocinaba toyota el mayor fabricante de coches del mundo

de autopistas y estamos dejando

la acción la iniciativa en manos de empresas que no creen que no creen en el futuro que representa la transición ecológica es más

hay muchas otras políticas que está desarrollando el gobierno que son exactamente en el sentido contrario que requiere la lucha contra el cambio climático fíjese en materia de residuos dijeron en el change the change los expertos que la gestión de residuos supone el cincuenta por ciento de las emisiones industriales bueno pues nosotros tenemos una incineradora que es el segundo mayor emisor

lo están construyendo las diputaciones sí pero es que las diputaciones están yendo por un lado y el gobierno está yendo por otro en agricultura la agricultura representa un tercio total de las emisiones la política forestal que estamos siguiendo es totalmente contrario a lo que debería seguirse si quisiéramos hacer frente al cambio climático

vuelos chárter desde nuestros aeropuertos con dinero del gobierno vasco para vacaciones estamos ejerciendo una movilidad inducida usted ha hablado de las dot espero que se cumplan las dot estamos poniendo polígonos en sitios donde no hay nadie estamos

alejados de los centros de consumo estamos construyendo autopistas vacías como la supersur también las diputaciones con dinero público

el acceso de los vehículos privados a los centros urbanos

eskerrik asko legebiltzar buru anderea no negacionista y no

frenar las energías renovables merecería la pena una reconsideración o una reflexión sobre lo que ha sucedido en el pasado en euskadi

por ejemplo en cuanto a lo que ha sucedido en la implantación de parques eólicos en euskadi y quién ha frenado la implantación de parques eólicos y la supuesta consecuencia que ha podido tener también para las empresas en todo caso

las energías renovables le diré hombre nosotros tenemos un ris tres de especialización inteligente con tres áreas de especialización inteligente uno de ellos es el de fabricación avanzada

las energías renovables como uno de los puntos fuertes dentro de lo que es el ámbito de las energías en ese ris tres de especialización inteligente que se complementa con el de biociencias y el de la salud y hablamos de energías renovables eólicas fotovoltaicas termo solares

y lo tenemos como segundo área de especialización inteligente entre las tres

la economía yo le he hecho referencia a lo qué es la economía circular y la apuesta por la economía circular que hacemos desde este gobierno y la apuesta prioritaria por lo que es también la transición energética lo he dicho en mi primera intervención como prioridad por lo tanto reconocer que hemos hecho poco

sí y que lo hemos de hacer más entre todas y todos con diligencia

también entre todas y todas y que hemos suscrito como grupo parlamentarios que apoyan al gobierno el pacto que aquí se alcanzó en semanas anteriores mire usted ha manifestado su interés por la conferencia internacional sobre cambio climático

en la parte principal de la coorganización estaban el gobierno vasco y el gobierno español en todo caso

una autoridad mundial presidente del instituto grantham sobre cambio climático y medioambiente

manifestó en el mismo congreso y dijo literalmente reconozco el liderazgo que el país vasco tiene en el tema del cambio climático

y desde luego no nos damos por satisfechos y vamos a mantener nuestro compromiso yo sí invito a una lectura y a una reflexión también por nuestra parte evidentemente como lo estamos haciendo en la estrategia de klima dos mil cincuenta y podremos comprobar

al liderazgo vasco en la lucha contra el cambio climático están fundamentadas beraz

superior a la infancia de forma transversal en todas las políticas públicas este acuerdo comprometía a un plan que debería haber presentado usted desde el mes de noviembre

a incorporar este principio y medias concretas en la ley de violencias machistas estamos en marzo de dos mil diecinueve y no hay plan horrexegatik ze betetze maila daramatza

no hay plan pero hay un proyecto de ley aquí ya en la cámara que contiene el instrumento más eficaz más poderoso que puede utilizarse para forzar a que todas las políticas públicas necesariamente tengan que contemplar una evaluación de impacto sobre la infancia y la adolescencia me estoy refiriendo

un proyecto de ley que establece ya las bases para que todo producto y todo proyecto que salga del gobierno tanto los proyectos que se remiten a la cámara los que se dirigen directamente al boletín oficial del país vasco todos durante su tramitación incorporen una evaluación de impacto

de niños y de niñas está ya en la cámara el proyecto de ley

esta es una cuestión ya interiorizada en el gobierno y ya los proyectos que están siendo objeto de tramitación incorporan esta previsión no voy a hablarle de los anteproyectos que todavía están en fase gubernamental le podría hablar de algunos de ellos que recogen incluso ese principio superior de niños

como principio rector de la propia ley de la actuación de la administración pública pero hay otro proyecto de ley también de carácter transversal

a propósito de la necesidad de que cuando el expediente sancionador afecte a una persona menor de edad se lo digo literalmente tenga que tener en cuenta el derecho de que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concernirle por tanto la norma está tramitada está aquí en la ley y hay una práctica ya establecida en el gobierno vasco de manera que todos los productos

evaluación de impacto sobre la infancia y la adolescencia que está siendo objeto de análisis ya

decir que igual no vemos los documentos de la misma manera anteayer

hablaban sobre la medición del impacto de las políticas públicas sobre la infancia y la adolescencia

una cuestión de enfoque y de voluntad usted manifiesta hoy que hay voluntad y yo le pregunto si de verdad considera que con lo que están haciendo

en primer lugar porque cuanto menos distinto

no hay nada que pueda excusar el atraso en un tema tan crucial entiendo que usted me plantea otra forma de hacerlo pero tenía un acuerdo con este parlamento un acuerdo

unos cuantos meses que tendría que haber estado aquí un plan que no existe un incumplimiento que además se basa en que en su día

genera cuanto menos tristeza en segundo lugar porque cuando antes empezaba hablando de voluntad política efectivamente ustedes contemplan en el proyecto de ley de disposiciones de carácter general en el artículo trece un epígrafe h que habla y cito textual de hacer evaluación del impacto sobre la infancia y la adolescencia en los términos que exija la legislación sectorial

sectorial lo que tenemos es en la aplicación de la ley de infancia no en el conjunto de las leyes desde luego nosotras estaremos vigilantes pero esperamos que esta medición

la infancia y la adolescencia que tienen el conjunto de las políticas públicas se haga ajustado al acuerdo seguiremos esperando seguiremos esperando el plan que se comprometió porque es desde luego lo que demandan

expertos es lo que se necesita y es lo que impulsábamos a este gobierno en principio ese plan tenía que contar con más visiones más allá

y desde luego vamos hacer todas las aportaciones que estén en nuestra mano como oposición pero consideramos que lo que se ha recogido

la infancia en el cajón de las políticas sectoriales y nosotras instamos y desde nuestra labor de impulso desde luego estaremos vigilantes y proponiendo para que eso

esperamos que ustedes como gobierno del bien común puedan cumplir con ese acuerdo y esperamos

un plan cuanto menos un cumplimiento detallado que solicitaremos por escrito besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora guanche efectivamente yo conozco esa resolución a la que hace usted referencia

en la que se recogía una fórmula singular califiquémoslo así de gobernanza dentro del gobierno para la articulación de una medida que se quería que fuera

el primer contacto que tuvo el departamento que presido con el ararteko pues lógicamente el ararteko le dijo lo que le tenía que decir que no está para colaborar con el gobierno sino para controlarlo

y que por tanto quisiera lo que considere oportuno pero que no estaba para colaborar fíjese lo que de original tenía aquel acuerdo del parlamento que estaba consensuado efectivamente pero que contemplaba un modelo de gobernanza muy original lo que sí le pareció bien al interlocutor del ararteko con quien mantuvimos contacto en aquel momento le pareció bien es que esto se articulara

que está ya aquí en la cámara si esto no está en vigor es porque la cámara pues bueno no ha tomado todavía cartas en el asunto y no ha impreso a este proyecto ley que ya está en la cámara la urgencia que seguramente tiene para que entre otros aspectos ese al que usted apunta pueda estar recogido pero claro la ley efectivamente habla de la ley sectorial pero transversaliza el requerimiento porque lo establece para todos los productos normativos que salgan del gobierno ya para todos no solamente sí sí

el procedimiento de elaboración de todas las disposiciones de carácter general sea cual sea el contenido que tengan por tanto no es ya una ley sectorial transversaliza el contenido

a partir de ahí todas las políticas públicas porque todas tienen que tener algún soporte normativo

es que alude a defectos formales a un acuerdo administrativo que se adoptó en el ayuntamiento de elorrio en junio del año dos mil quince y que hacía referencia a la aprobación definitiva del plan parcial

pero en ningún caso queda suspendida ni anulada la recalificación del suelo eso en primer lugar por qué porque hay que tener en cuenta y para ello sprilur como promotora de ese suelo industrial lo tiene en cuenta

esa resolución y esa resolución desestima por improcedentes y es importante los argumentos de la parte recurrente

que trataban de poner en entredicho la legalidad y eficacia de la ordenación pormenorizada contenida en las determinaciones del plan parcial por tanto queda anulada formalmente

desestima esos argumentos de la parte recurrente por tanto a lo que me preguntaba le reitero por supuesto

válido necesario y lo vamos a seguir promoviendo eskerrik asko

ha dicho usted señora tapia y a eso quería yo llegar que este suelo es necesario

no lo es no lo es porque aquí lo que subyace es precisamente porque llevan más de casi veinte años litigando para conseguir

que no tiene ninguna necesidad en elorrio hay un montón de hectáreas de suelo industrial ahora mismo en desuso fytasa lince

varias hectáreas de suelo en desuso y ustedes no lo han contemplado van al suelo de alto valor

en elorrio y no lo necesitan tampoco en general en euskadi fíjese apenas a diez kilómetros más allá o quince está bergara en bergara tienen ustedes el polígono larramendi con exactamente

y lo tienen con un seis por ciento de ocupación y se han gastado desde dos mil diez más de cinco coma cinco millónes de euros que están ahí muertos de risa

por qué van a recalificar nuevo suelo si no es necesario acabamos de escuchar al lehendakari las nuevas

unas políticas del suelo diferentes unas políticas del suelo para reutilizar el suelo

dice lo mismo la diputación de bizkaia dice lo mismo y sin embargo ustedes erre que erre a recalificar un suelo que no es necesario

es un despilfarro de recursos públicos que está teniendo lugar con la excusa

el suelo fue comprado por el famoso antón zubiaurre aquel que se dedicaba a comprar suelo

antes incluso de que se hiciera un informe de alternativas sobre si era necesario o no

enorme en sprilur con más de sesenta millónes de déficit

diez años que no tiene fin ustedes a día de hoy han tenido que reducir después de esta sentencia el valor contable de pulla azkarreta de cuatro coma cinco millónes a dos millónes porque

no tiene valor ni de dos millónes ahora mismo vale cero vale cero y además no es necesario es decir aunque se lo gasten y lo construyan se va a quedar vacío entonces mi pregunta es por qué están haciendo eso por qué no utilizan

esta sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco para cambiar las dinámicas que a día de hoy están siguiendo cambien el rumbo de sprilur empiecen a reutilizar terrenos industriales ya existentes en los municipios

innecesariamente en aquello que no va a tener ningún uso ni lo tiene ahora ni lo ha tenido antes ni lo va a tener en el futuro no vayan

no vayan contra el municipio y vayan a favor de otra gestión del suelo industrial gracias eskerrik asko becerra jauna

pero lo más importante en este caso señor becerra es que en esta resolución judicial contrariamente a lo que ocurre en otras ocasiones

al hecho que se está recurriendo y sobre el que se anula un acto administrativo se entra al fondo y en el fondo la resolución judicial no habla de que se esté haciendo mal sino que precisamente desestima todos y cada uno de los argumentos de la plataforma recurrente cosa que no es nada habitual entra por tanto a la forma y al fondo qué vamos a hacer puesto que consideramos que es importante tener suelo preparado además del ya vamos a reiniciar el procedimiento siendo absolutamente escrupulosos con todos y cada uno de los procesos necesarios con todas y cada una de las tramitaciones necesarias los informes preceptivos los informes vinculantes y siendo insisto

y le adelanto que ya hemos introducido y usted lo sabe perfectamente en el ayuntamiento de elorrio con fecha quince de noviembre el documento de evaluación
ambiental estratégica de ese plan parcial para reiniciar todo el procedimiento eskerrik asko eskerrik asko

desde mi escaño presidenta con su permiso nos gustaría preguntar a la consejera

previsión tiene de cumplir su compromiso de presentar la nueva ley de educación en este año de dos mil diecinueve eskerrik asko

por ello tal y como está previsto y planificado y no entrando dentro del marco de restricciones de la normativa electoral para las campañas institucionales durante los periodos electorales es un compromiso de mi departamento seguir dando pasos para el cumplimiento de las actuaciones definidas en el programa de gobierno

que nos ayude a seguir avanzando y profundizando en la calidad del sistema educativo vasco eskerrik asko

su respuesta y estoy segura de que su esfuerzo irá

van pasando los días y nuestro grupo empieza a pensar que vamos a andar cortísimos de plazo y teniendo en cuenta que el año que viene es un año especial puesto que será lo que solemos llamar un año electoral nos tememos que esta ley pueda quedar para el año que viene no quiero ser

un pájaro de mal augurio pero nos está empezando a preocupar eso

desde el principio del mandato conocíamos los quince días de la campaña del veintiséis de mayo eso era algo ya sabido las municipales y también tenemos que tener en cuenta que las generales que son sobrevenidas sin duda pues la campaña va a estar durante no las vacaciones pero sí días más o menos inhábiles de la semana santa y la semana de pascua con lo cual no nos parece

que sea un retraso que se debiera ser muy significativo

tenemos dudas y por qué tenemos problemas

creo que quedan cuarenta y nueve días laborales no quedan más menos de dos meses cerca de mes y medio

a las que nuestro grupo no se está sumando porque entiende que son iniciativas que se deben debatir

una iniciativa del grupo eh bildu para crear una ponencia

de alguna forma eso debiera estar incardinado también en el debate de la nueva ley

unas preocupaciones comunes que siguen sin resolver que son las siguientes la estructura del sistema educativo vasco la financiación del sistema educativo vasco la atención

de los alumnos y la mejora en resultados y por tanto la excelencia yo creo que esos son cuatro retos que todos compartimos y que no hay duda de que se han intentado resolver pero un decreto es un instrumento de gobierno una ley es un instrumento legislativo de todos los que estamos aquí todos queremos poner nuestro grano de arena para que se solucione

es muy preocupante la incidencia de la demografía en el sistema la planificación de la renovación de los centros teniendo en cuenta esa demografía y como usted bien sabe la enseñanza del inglés

temas que creemos que de una forma u otra se deben abordar en la ley nuestro grupo tiene vocación de participar

sin duda se puede gobernar pero la legislación compete a este parlamento por eso nuestra gran preocupación de no poder llegar

continuaremos dando pasos para cumplir los compromisos marcados en lo relativo a la aprobación de una ley vasca de educación

sin coartar el necesario debate en esta cámara que sin duda enriquecerá el nuevo marco de referencia

afecte al trabajo que estemos desarrollando en todos estos años en euskadi nos hemos guiado por una única ley de educación basada en el consenso

como le digo señora bengoechea seguimos dando pasos hacia la nueva ley me gustaría recordar en este punto que el pasado veintidós de octubre trajimos a la comisión de educación de esta cámara el documento acuerdo por la educación bases para el acuerdo un documento fundamental y con una vertebral y básica de la nueva con ciento veintidós resoluciones aprobadas por la mayoría de esta cámara es nuestra obligación y nuestro compromiso aprovechar la oportunidad de construir sobre la base de dicho acuerdo

avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas desde el departamento estamos trabajando para dar cumplimiento

una futura ley propia de educación que recoja los principios inspiradores

esaten zen que existía una grandísima preocupación por la insuficiencia de las medidas adoptadas por la administración para evitar la segregación y la situación que se daba en los centros eta hau da gutuna erantzunik ez no ha habido respuesta

llevó después de esto una moción al ayuntamiento de bilbo para paliar los posibles efectos de la segregación y su partido además de votar en contra le pasó la pelota a usted como ahora y en el acta de aquel pleno el concejal de educación dijo correspondía solamente a su departamento implantar medidas para evitar casos de segregación y guetización viene en el acta no me lo estoy inventando yo

si usted pero yo conozco de primera mano la situación por lo menos de tres barrios rekalde mire la escuela está totalmente estigmatizada por falta de apoyo

eskola horri no dotáis de los recursos que la escuela

necesita y qué decir de otxarkoaga donde todavía existe única y exclusivamente el modelo a así es imposible

diverso euskaldun en el que nadie se sienta discriminado su departamento y los departamentos homólogos del ayuntamiento de bilbo no hacen nada absolutamente nada

gurasoei eta auzo horietako jende guztiei gurekin kontatu ahal dutela por qué porque bildu cree en las escuelas de barrio y seguiremos apostando por la diversidad y en la inclusión a pesar de la inacción de su departamento

señora goirizelaia somos conscientes que aunque estas decisiones de política educativa va en la buena dirección no serán suficientes para revertir algunas situaciones de desigualdad o desequilibrio que se observan en algunas zonas como usted ha demostrado de bilbao

además teniendo en cuenta que las familias de mayor vulnerabilidad social tienden a establecerse en determinados entornos o barrios

el departamento considera necesario plantear intervenciones integrales dirigidas a estos entornos y potenciar la colaboración de diferentes servicios y profesionales así como de entidades sociales

hori argi dago este parlamento plantea que se cree una mesa de trabajo y en vez de esa mesa de trabajo se monta una consultiva pero sin hacer a esas consultas que sí que duran meses se hace

una irresponsabilidad absolutamente en mayúsculas lógicamente la comunidad educativa se revela se ponen en huelga y

yo pregunto cuál va a ser el próximo viraje diría incluso que dejen de marear porque se está utilizando a todo un sector a toda la comunidad escolar a trabajadoras

para tomar decisiones vertiginosas sin un sentido claro

yo pregunto otra vez si se piensa seguir gobernando si tenemos un plan un plan b o si hay un plan siquiera algo así tan sencillo de momento tenemos a toda la comunidad en pie de guerra y no solamente a la comunidad

había una huelga estudiantil contra el cambio climático pero es que los jantokis y las jangelas también

los jóvenes están pidiendo responsabilidad política y social a las personas que estamos aquí a las y los políticos nos están diciendo que las cosas hay que hacerlas de otra manera y en los jantokis no se está haciendo así lo tengo muy claro y lo tenemos muy claro es verdad que estamos hablando de un modelo pero hoy estamos hablando de las formas y estas formas no deben ser así

y porque las decisiones son unilaterales del gobierno en definitiva

erabakiak le pedimos responsabilidad una cosa que siempre se pide bueno

nada más que eso entramos en una nueva fase es urgente la calidad de comida es bastante escasa la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras también

escolares es bastante yo diría que incluso crítica

en sus manos y además es una fase yo diría que de negociación como ha sido hasta ahora

espero que se escuche que se ponga encima de la mesa lo que están pidiendo y desde luego que se tomen medidas así el momento del cambio en los comedores yo diría que es aquí y ahora pero necesitamos la opinión de trabajadoras de ampa en definitiva de toda la comunidad educativa que son los que lo sufren

si no seguirá dando tumbos y hoy a la mañana hemos oído aquí que se surfeaban las olas yo espero que usted se ponga a surfear vaya por la parte de arriba pero que no se caiga con la tabla abajo

como le he indicado en mi anterior intervención el departamento de educación no

fruto de la reflexión compartida en el marco de la comisión de trabajo creada durante los meses de andadura desde su constitución

y organismos implicados en la materia las diferentes experiencias abordadas han permitido que los miembros que componen la comisión se hayan formado una opinión contrastada y objetiva en torno a la viabilidad y a los posibles beneficios de los diversos modelos de gestión de los comedores escolares

las asociaciones de desarrollo rural asociaciones como justicia alimentaria iniciativa como gure platera gure aukera jangurie o berton bertokoa

o empresas que trabajan en el sector de la restauración para colectividades asimismo también se ha escuchado la opinión de varios organismos públicos como por ejemplo la junta asesora de contratación pública para exponer todas las cuestiones relativas a la contratación administrativa o el departamento de salud encargado de aclarar aspectos tan fundamentales como son el control sanitario o la seguridad alimentaria

un año después hemos preguntado lo mismo y la respuesta a ese cambio a esa solicitud

la propuesta provisional favorable para aceptar una nueva línea

de cuatro años qué razones justifican tal decisión eskerrik asko

el centro ya preveía esta situación y en noviembre del dos mil diecisiete en plazo y forma había solicitado un aumento de planificación para poder dar cabida a todas las solicitudes

provisional presentó alegaciones y en marzo del dos mil dieciocho se le volvió a denegar de forma definitiva en el informe de la dirección de centros y planificación se decía textualmente lo siguiente

ni la del centro público para no crear excesivas plazas libres solo en el centro público

en noviembre el centro vuelve a solicitar el cambio de planificación

ya que en el municipio se superan los ciento veinte alumnos en esa edad lo cual

y otro grupo en el nivel de tres años ya que se prevé que ocurra lo mismo que en el año anterior porque en esta edad también hay niños y niñas suficientes para planificar otras seis aulas en el municipio

hori gertatzen ari da es un tema complejo son conceptos diferentes parecidos órdenes decretos complejos que esconden una cada vez más desigual acceso a la educación son en estos procesos de matriculación en este caso tenemos ordizia tuvimos recientemente

se producen y favorecen como el caso de álava con ese cambio vergonzoso de última hora

educación concertada y ese favorecer a la segregación escolar steilas denunció irregularidades en la matricula del dieciocho y diecinueve en ordizia

una mañana a este parlamento ustedes la elaboran y ustedes la están incumpliendo y cada curso es lo mismo en enero se planifica en enero se matricula perdón y si hay en un nivel y en un modelo más solicitudes se

y se adjudicó otro centro en este caso en

para que si jakintza tenía cincuenta plazas en educación infantil y hubo once solicitudes más que se baremaron para ir a la ikastola

de lazkao si luego preguntamos y la respuesta es que acabaron matriculados

qué ha pasado en ese intervalo y sabe cuál es

provisionalmente ha autorizado esa aula más cuando había sitio

solicitudes el alumnado está ajustado a la planificación a esas cinco líneas actualmente existentes en

lo que pasa lo que pasa es que no se están matriculando en la educación pública eso es lo que está pasando y eso es lo que hay

una sola aula más sobre todo si hay sitio en la escuela pública y en este caso estamos hablando

porque si jakintza tenía doce solicitudes más y se baremó como decía a lazkao había sitio como le digo

pública y no hay necesidad como decía al principio de más líneas en ordizia el problema es otro y usted lo ha dicho antes referido a la segregación

a un treinta y siete por ciento la concertada ha pasado de un seis por ciento a un seis por ciento
esa es la realidad de ordizia eso es lo que esconde los datos eskerrik asko martíinez zatón jauna

de manera que queden tres grupos en jakintza y otros tres en urdaneta con plazas libres en ambos centros

sakonduz en marzo de dos mil diecinueve se resuelve cambiar la planificación también para el nivel de tres años de manera que queden planificadas seis aulas en el municipio con plazas libres
en los dos centros existentes eskerrik asko uriarte

señoras consejeras señor consejero bien señora murga pues

en su nueva labor y bueno desde luego pues tendrá

y vamos a hablar de ello vamos a entrar directamente hablar de la farmacia en este caso de una ausencia que hemos valorado nosotros la ausencia de la farmacia

importante labor cada día más creciente de la farmacia comunitaria de la oficina de farmacia en el entronque con la atención primaria

con la colaboración con la asistencia médica con la asistencia primaria en definitiva con la atención primaria hemos visto que después de haber confeccionado el departamento pues hemos visto recientemente ahora en febrero justo de este mismo año hace pocas semanas

estratégico sobre la atención primaria hemos visto que y hemos coincidido además con el sector porque nos han trasladado alguna

en relación con esa falta de colaboración o esa falta de integración de lo que es la farmacia sí que se habla de la farmacia de atención primaria pero lógicamente en el puro sentido de lo técnico dentro del

de menos más acciones o más estrategias incluso

de la atención primaria y dentro de la atención a los pacientes es decir faltaba algo más desde nuestro punto de vista ya veremos cómo lo analizan desde

pero creo que incluso alguna línea estratégica podía haberse apuntado en ese sentido es decir permanentemente como los expertos están hablando dentro de lo que es la ordenación de la farmacia de la farmacia

está adquiriendo en un proceso y en una situación en una realidad de envejecimiento de la población de

afecciones crónicas cuando se habla de la adherencia

de la información de la prevención el papel de la farmacia del farmacéutico conecta precisamente de una manera esencial con esas necesidades que también tiene que desarrollar la atención primaria y los profesionales que la atención primaria establecen esas líneas de asistencia a la población

papel el documento precisamente el documento

de elementos que lo componen a parte de la introducción o del marco

algunas cifras es decir pero las líneas estratégicas hay están siete líneas estratégicas efectivamente interesantes y de análisis

efectiva y estratégica también el papel de la farmacia comunitaria

proponiéndolo en este parlamento en ese análisis que hacemos nosotros y que han hecho también los colegios y los farmacéuticos en relación con

insatisfacción o gran insatisfacción según por donde se mire además una vez de que el propio gobierno

reciente respuesta de hace ni una semana

del departamento a este parlamentario es decir decía que la farmacia comunitaria es un agente sanitario accesible y cercano al paciente

agente cercano accesible cercano al paciente es decir elemento fundamental que conecta con las necesidades

de una manera esencial bien hemos visto pues a la vez de preparando la iniciativa como pues desde luego

las organizaciones expertas las asociaciones internacionales de farmacéuticos o los expertos que aquí trabajan en la universidad cómo

comunitario tiene mucho que aportar en ese desafío asistencial en una labor coordinada

profesionales de enfermería de otro tipo de actividades y en ese sentido

en lo que son esas necesidades y esa exigencia de que cada día estén más presentes eso lo hemos visto muy claro también en unas jornadas

que la agrupación farmacéutico europea celebraba hace poco tiempo en españa se seguía hablando

sistemas de política de asistencia sanitaria y en relación con mejorar la atención primaria para responder a esos problemas de salud hablaban del papel de los farmacéuticos cómo se están consolidando en funciones en ámbitos de la promoción de la salud de la cronicidad

entender que tienen un papel esencial de mano de las necesidades que la atención primaria expone esas son algunas de las cuestiones es decir

el documento y la estrategia de atención primaria

mediados de febrero hemos recibido hemos recogido esa ausencia o esa insatisfacción podía haberse establecido de una manera más estratégica o de una manera en cualquier caso nos dirá

el papel de la farmacia comunitaria y del farmacéutico en relación con esa

de prevención y de participación es decir estamos viendo día a día cómo se involucran cada día más los farmacéuticos

como francia en cuestiones que tienen que ver incluso con la vacunación incluso con temas que

que se integran perfectamente en lo que es la atención primaria o sea que

que presenta el gobierno es decir incluso expertos hablan del papel de las farmacias comunitarias

en el control por ejemplo de enfermedades respiratorias papel relevante en relación con algunas cuestiones que tienen que ver incluso con el diagnóstico precoz con la detección con la deshabitación tabáquica con el seguimiento de pacientes crónicos con la formación

en ese sentido por parte de universitarios especialistas en este tema cómo entroncan

como entroncan el papel del farmacéutico comunitario con el papel de la asistencia

en este caso de la atención primaria en cualquier caso señora consejera quedo
a sus explicaciones muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko murga anderea zurea da hitza

por la disposición de todos en este primer día se lo agradezco

en respuesta a la pregunta que me ha realizado señor barrio comenzaré señalando que comparto con usted

juegan un papel esencial en el cuidado de la salud de las personas en más de una ocasión nos habrá escuchado defender que para nosotros el departamento de salud la farmacia es un elemento fundamental en la calidad y eficiencia global del sistema de salud de hecho en euskadi llevamos años apostando por un modelo de gestión de la prestación farmacéutica

la farmacia comunitaria y su integración con el resto de agentes del sistema de salud en coordinación con la atención primaria con la atención hospitalaria y con los servicios sociales en línea también con la estrategia de integración sociosanitaria vasca y a través

que aporten valor así en euskadi hemos sido pioneros en el desarrollo de este tipo de programas

y con las oficinas de farmacia desde inicios de los años noventa en ellos

campañas en el ámbito de la salud pública y programas de un carácter más asistencial a través de convenios específicos me van a permitir que brevemente

y los colegios oficiales de farmacéuticos del país vasco venimos colaborando porque demuestran la importancia que siempre hemos otorgado en euskadi a las farmacias y sus profesionales como agentes de salud de primer orden

año en el que el departamento de salud firmó junto con los colegios oficiales de farmacéuticos un convenio de colaboración para la prevención del sida

sigue vigente y plenamente operativo el dieciocho de febrero del dos mil nueve se firmó un anexo al mencionado convenio cuyo objetivo fue la realización de una prueba piloto que permitió evaluar la conveniencia de facilitar el acceso a la población

vih a través de las oficinas de farmacia

de esta prueba piloto fue favorable y en estos momentos son cincuenta las farmacias que participan en el programa el año dos mil dieciocho

de este tipo de test además de este convenio que goza de una alta valoración social en diciembre

se firmó también el primer convenio de colaboración entre el departamento de salud y los colegios oficiales para el suministro de metadona a través de las oficinas de farmacia a personas dependientes de opiáceos desde entonces

prorrogando anualmente también y para este año dos mil diecinueve ya se ha firmado su continuidad por otra parte

se firmó el convenio de colaboración entre el departamento de salud y los colegios farmacéuticos para la mejora

en personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria

claramente alineado con las estrategias de vejez cronicidad y dependencia como con la coordinación sociosanitaria es un claro ejemplo de la integración de la oficina de farmacia como un agente más del sistema de salud en coordinación con los servicios sociales y de hecho en este momento estamos atendiendo a ochocientos cuarenta y cuatro personas

y en este marco de acuerdos y colaboración me gustaría destacar también un cuarto convenio que está dando muy buenos resultados y que iniciamos en octubre del año pasado con un programa piloto en pacientes

presentan o padecen diabetes tipo dos el objetivo de este programa es mejorar el uso de los medicamentos y los resultados en salud

mediante una atención fármaco terapéutica integral potenciando el papel asistencial de las farmacias comunitarias como establecimientos sanitarios y fortaleciendo los canales de comunicación entre los profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales a través

que ha supuesto un importante esfuerzo desde el punto de vista técnico pero que considero y estoy segura de que el señor barrio estará de acuerdo en que se trata de una acción importante para avanzar desde el esfuerzo conjunto y la colaboración en la mejora de la salud de las personas en este caso de las personas que padecen

eskaintzen dio farmaziari como han podido comprobar son muchos años ya de colaboración y trabajo conjunto sin embargo departamento de salud seguimos avanzando en esta línea

en la estrategia de fortalecimiento de atención primaria que hemos presentado recientemente y que en breve espero poder presentar con detalle también en este parlamento

a la farmacia un apartado especial que plantea acciones concretas en el propio consejo asesor de atención primaria uno de sus miembros es un profesional farmacéutico

así en el marco de esta estrategia general de la atención primaria esta estrategia cuenta con siete líneas y treinta y cinco acciones para mejorar y potenciar el servicio que presta la atención primaria

incluida la farmacia actualmente en euskadi contamos con un buen modelo de atención primaria eficaz viable y bien valorado por la sociedad vasca pero somos también conscientes de que es necesario fortalecerla y para eso la estrategia

y debatido con distintos agentes en los últimos meses plantea un incremento de recursos incremento en el personal incremento en la inversión para la modernización de centros e incremento de recursos para la actualización de los sistemas tecnológicos en el ámbito organizativo estamos

para desburocratizar la tarea de médicos y personal de enfermería para que de esta forma

a la atención al paciente y acorde a la estrategia estamos trabajando sobre el modelo de agenda para facilitar que puedan organizar mejor su trabajo

el personal de enfermería tendrá la opción de indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios

del sistema sanitario en este contexto planteamos también abordar las funciones

incorporando a las funciones ya consolidadas nuevas derivadas de una atención integrada tal y como recogemos en la estrategia las funciones del farmacéutico de atención primaria complementan a aquellas de los miembros del equipo y está demostrado que tienen un gran impacto seguimiento fármaco terapéutico de los y las pacientes en especial en la prevención de resultados negativos asociados a la medicación

por lo tanto como ve señor barrio efectivamente la farmacia siempre ha tenido y tendrá un papel muy importante no solo en el ámbito de la atención primaria sino
en el conjunto del sistema sanitario vasco eskerrik asko eskerrik asko murga

gracias presidenta gracias señora consejera por sus explicaciones y sí compartimos que la farmacia y los profesionales de la farmacia

como esencial como muy importante como importantísimo lógicamente y además eso reconociendo el valor de su papel vemos que en el documento sobre la atención primaria o sea vuelvo a repetir lo que he dicho antes hay un déficit

se habla no en línea estratégica pero sí en puntos se habla

conjuntamente con los médicos con el personal de enfermería

general el farmacéutico el de la oficina de farmacia el farmacéutico comunitario en relación con este documento porque tiene o sea

de colaboración esencial en relación con lo que la atención primaria tiene y en relación con el resto de líneas estratégicas de las que se habla de los equipos de otros papeles el papel de la enfermería el papel de la medicina de familia

el papel el papel del farmacéutico comunitario aparte del farmacéutico estrictamente de atención primaria que tiene su labor y su función

social asistencial de cercanía con el paciente que ustedes mismos reconocen

echamos un poco de menos somos conocedores desde luego de la implicación del farmacéutico comunitario de la persona que los farmacéuticos y las farmacéuticas que tienen oficina de farmacia cómo

su posibilidad de ser corresponsables con la administración de ampliar las posibilidades de hacer cuestiones usted ha hablado de muchos de esos convenios y

desde ese ámbito desde esa gestión privada que ellos tienen desde su apuesta por ese

cómo quieren ellos también compartir escena y esfera pública dentro de esa asistencia habíamos hablado antes de muchas de esas

con la implicación incluso en actividades como

o sea elementos importantísimos de detección precoz algunos de ellos pero vemos que hay una insatisfacción

atención primaria nosotros queremos completarlo y me parece extraordinario que la señora consejera venga a la comisión para explicar con detalle

cuestiones ciertamente interesantes pero nosotros entendemos que se podría completar en esa pata de la que yo le hablo porque

indefinición en relación con este documento y ya que es un documento de carácter estratégico tendría que ser

y que no se escapase ninguno de los agentes que participan

directa o indirectamente pero que son agentes esenciales

en la moción que traeremos al pleno consecuencia de esta interpelación trataremos de profundizar

de cómo reflexionar sobre él de cómo integrarlo

pero lo haremos próximamente esperemos que podamos estar receptivos y esperemos que así su explicación ante la cámara en relación con el documento de atención

factor más decidido que no solamente defina el papel

no consta en este documento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio dado el interés que la farmacia comunitaria despierta en usted

me gustaría también recordar en este cámara que en estas dos últimas legislaturas

hemos planteado un carácter estratégico a la hora de plasmar nuestra apuesta

de hecho se ha incorporado el objetivo de integración de las oficinas de farmacia como agentes de salud en los programas de gobierno con iniciativas específicas en concreto en el programa de gobierno de la once legislatura se ha incorporado el compromiso número ochenta y dos

con las iniciativas uno y dos consolidación de la integración de las oficinas de farmacia como agentes de salud en el sistema sanitario público vasco impulso de una adecuada atención farmacéutica a todas las personas atendidas en residencias de personas mayores y centros socio sanitarios de euskadi por otra parte el plan de salud para euskadi dos mil trece dos mil veinte en su área prioritaria

incorporan el objetivo dos punto dos uso adecuado de fármacos fomentar el uso adecuado de fármacos a través de una actuación coordinada e integrada

y farmacias en especial para los pacientes como he mencionado anteriormente polimedicados que son aquellos que más se pueden beneficiar y de aquellos fármacos que requieren un seguimiento especial

además de estos objetivos se han incorporado a nivel de las líneas estratégicas del departamento de salud y osakidetza y es más

en la reunión que mantuvo el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete con los tres presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos de euskadi y el presidente del consejo general de colegios farmacéuticos de españa

la apuesta vasca por el modelo de farmacia comunitaria destacó el papel fundamental de la farmacia como colaborador importante de los planes de mejora de la asistencia sanitaria como un claro ejemplo de éxito en la colaboración público privada

por continuar con su desarrollo con la puesta en marcha de programas de atención farmacéutica que aporten valor al sistema sanitario

efectivos de manera que complementen las necesidades del sistema de salud en aquellos ámbitos en que resulte de interés para ambas partes de cara a ofrecer un servicio de calidad a los y las pacientes y la sociedad en general uste dut barrio jauna

eta beste eremuetan ere no me extenderé mucho más dado que creo que ha quedado claro en mi respuesta que la farmacia y sus profesionales

en el entramado sanitario vasco en la atención primaria desde luego y en el resto de ámbitos también por eso solo añadiré para finalizar

aprobó el pasado veintiséis de febrero un decreto que regula los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores este decreto establece un nuevo modelo de la prestación farmacéutica más eficiente y seguro que pretende incrementar la calidad asistencial en el ámbito de la farmacia

de euskadi un ámbito para nosotros tan cercano como la atención primaria y que vuelve a demostrar la importancia que le damos al ámbito farmacéutico y a su gestión hemos realizado un trabajo importante con frutos muy positivos

y que esperamos contar con la misma implicación y ayuda que siempre hemos tenido de todas las partes implicadas y por supuesto también de ustedes

acuerda la suspensión de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de desarrollo profesional convocadas por las resoluciones en su momento dictadas en el año dos mil once

también la suspensión de los nuevos reconocimientos de desarrollo profesional como usted sabe señora consejera porque además este punto ha sido tratado al principio de la sesión

esta resolución ha sido ampliamente recurrida no solo por sindicatos sino también por particulares y que ha dado lugar a varios pronunciamientos sí que es cierto que la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco está recurrida en casación es una sentencia que la tiene que dictar la propia sala

hay otro pronunciamiento ya del tribunal supremo inadmitiendo el recurso interpuesto por

como decía la primera sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco

recurrida habla claramente de un reconocimiento

y no solo ello sino que este reconocimiento del desarrollo profesional lleva aparejado el abono de las cantidades correspondientes que están pendientes

de la carrera profesional tiene una absoluta cobertura legal

correspondientes por lo tanto estamos hablando de un derecho claramente consolidado y también en euskadi por eso le preguntamos señora

este fallo de los tribunales que pone en evidencia

estos últimos años que no ha posibilitado el desarrollo de la carrera profesional de aquellos empleados

aquellos que no han podido hacerlo por la resolución correspondiente del dos mil catorce pero que en definitiva estos fallos ponen en evidencia que no se ha permitido y se han frustrado expectativos concretas de empleados que pretendían

profesional reconociéndolo como derecho con el abono como le decía de las cantidades correspondientes eskerrik asko garrido

epaia ez da behin betikoa itxaron dezagun beraz lo repetiré tal y como he hecho al principio de la

siempre han respetado las decisiones de los tribunales y no vamos a cambiar ahora estoy segura de que usted compartirá conmigo

este respeto a la labor judicial pero de momento en esta ocasión no estamos ante una sentencia firme

el recurso de casación autonómico planteado ante este mismo tribunal como usted misma ha mencionado por lo tanto vamos a esperar sin embargo

se mantiene suspendida en aplicación de la ley de presupuestos de los años dos mil doce dos mil trece y dos mil catorce es más ese año en dos mil catorce

sin embargo el acuerdo no fue posible y desde entonces la carrera profesional se ha mantenido congelada

han sido innumerables sin embargo la respuesta sindical a cualquier posible negociación siempre ha sido no sin embargo

ya anunció en la mesa sectorial de sanidad su intención de retomar el abono de la carrera profesional desde enero del dos mil diecinueve

esto sí que es una evidencia de la actuación del departamento de salud

y no la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia del país vasco el trece de marzo hay que esperar

y en consecuencia se actuará eskerrik asko eskerrik asko murga

gracias señora presidenta eskerrik asko sailburu andrea lo que pasa es que la pregunta es muy evidente señora consejera por qué se han generado y se han frustrado mejor dicho esas expectativas de derecho

expectativas a miles de profesionales de dos mil doce por qué se dicta esa resolución del dos mil catorce que paraliza las convocatorias que estaban en curso por qué se está dilatando el pago de estos plazos cuando obviamente vamos a esperar pero ya saben ustedes el pronunciamiento del tribunal supremo en qué sentido ha ido inadmitir el recurso interpuesto por

y el otro recurso lo va a resolver la misma sala y el primer recurso y la primera sentencia ya hemos visto en qué sentido ha ido no solo

reconocimiento de que se abonen esas cantidades que se deben por qué otras comunidades autónomas con menos recursos han reconocido la carrera profesional señora consejera
por qué se ha impulsado a los afectados a los tribunales porque al final se les ha imputado cuando se sabe que se les va a tener que pagar eskerrik asko

señora garrido nuestra voluntad de abonar la carrera profesional ha sido clara cuando la economía del país vasco así lo permitiera y debemos reconocer que es ahora

para el conjunto de la sociedad vasca es cierto que para este ejercicio contamos con unos presupuestos prorrogados pero no es menos cierto

ha demostrado que su voluntad de recuperar la carrera profesional para este año dos mil diecinueve es un hecho

vamos a abonar este complemento a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que les corresponda y mientras también vamos a esperar a la resolución

autonómico planteado por osakidetza ante el tribunal superior de justicia del país vasco vamos a esperar y una vez que se resuelva

hoy se cumplen tres meses desde que los y las trabajadoras de la biblioteca ubik

iniciaron una huelga reclamando unas condiciones de trabajo dignas desde el veintidós de diciembre las y los mediadores

sin ninguna propuesta que ayude a desbloquear la situación ni por parte de tabakalera de la empresa subcontratada la biblioteca ubik es uno de los servicios más usados por la ciudadanía donostiarra y lleva desde entonces cerrada en este periodo de tiempo solo ha habido siete reuniones entre las y los trabajadores y la empresa subcontratada por tabakalera sedena

no ha participado y lo que aún nos parece más grave no ha habido ninguna propuesta que se acercara ni de lejos a las peticiones de las y los trabajadores esta actitud pone en entredicho la disposición tanto de la empresa

para solucionar el conflicto las trabajadoras subcontratadas que dan servicio de cara al público en la biblioteca reclaman soluciones además de diálogo tan solo quieren llegar a un acuerdo que ponga fin a la precariedad a la que se ven

que seguro desconoce no pueden disfrutar de las vacaciones cuando quieran sino que se encuentran distribuidas en sus semanas de descanso propiciadas por el trabajo

de novecientos noventa euros por mencionar dos de las condiciones laborales que derivan del convenio que se les aplica que es el del ocio educativo y animación sociocultural

desde elkarrekin podemos no entendemos cómo no se toman medidas y por qué hasta el momento

en una infraestructura cultural pública que está bajo su responsabilidad porque como usted bien sabe el consejo de administración de tabakalera está conformado por representantes tanto de la diputación de gipuzkoa

como del gobierno vasco entre los que usted mismo se encuentra y algunos de esos consejeros han trasladado

son malas y hay que mejorarlas sin embargo el pasado mes de enero en el mismo consejo de administración donde se aprobó un presupuesto de seis millónes de euros

no se aprobó ni una propuesta concreta para encauzar la situación de las trece mediadoras de ubik en huelga y poner fin al conflicto laboral que usted tendrá algo que decir al respecto de este asunto desafortunadamente una vez más se reafirmaron en que es un conflicto que hay que resolver entre la empresa y la plantilla a nosotras esta actitud nos parece irresponsable y nos hace dudar

están bloqueadas nos parece interesante importante

debiera participar en las negociaciones activamente encauzando y participando en el acuerdo entre las trabajadoras y la propia empresa y la propia tabakalera

no es el primer conflicto en euskadi relacionado con las condiciones de empleo en diferentes infraestructuras culturales ni será el último a la vista de las políticas que implementa su departamento

donde usted tiene responsabilidad directa como es el museo guggenheim de bilbao las dieciocho personas de los departamentos de educación y orientación del museo guggenheim de bilbao en plantilla

la compensación de festivos trabajados y la subrogación de sus contratos le parecen a usted que no eran esas condiciones de trabajo dignas en un museo que recibe dinero público si la memoria no me falla en torno a seis millónes de euros anuales

ante las justas demandas de estas trabajadoras se lo recuerdo señor zupiria la respuesta de la fundación

que había llevado a cabo durante dos años la externalización de esos trabajos

del trabajo que estaban realizando sus trabajadoras lo que supuso el despido inmediato de la mayoría de estas personas otro ejemplo de precariedad se ha dado en el museo

de bilbao tenían unas condiciones laborales lamentables salarios de miseria inseguridad en el empleo después de una huelga de cuarenta y uno días consiguieron pasar

a veinte mil quinientos más los trienios lo que en la mayoría de los casos una subida salarial por encima del cien por ciento además se reconocía la petición de la plantilla para llegar a la cifra de mil doscientos euros netos mensuales por catorce pagas al año

se logró el reconocimiento de la antigüedad con su correspondiente montante económico en la figura de los trienios y este acuerdo

de la lucha mantenida por las trabajadoras por cierto en todos estos casos que le he mencionado no solo

hacia las condiciones laborales precarizadoras de las trabajadoras de museos y otras infraestructuras sino que también

y les tienen que obligar lo cual es bastante triste es posible que las administraciones y usted en particular

que imponen a trabajadoras en estos espacios y como ya le he expresado en otras intervenciones el problema radica en el modelo cultural que usted y su departamento están desarrollando en euskadi

debería estar centrado en la cultura de base en el espacio público como lugar principal para el desarrollo de la cultura viva comunitaria en pueblos y ciudades y no en la tendencia a convertir la cultura en un producto mercantilizado y espectacularizado para el consumo el ocio y el turismo del gran museo y el macro evento

en euskadi un modelo que no genera empleos de calidad al contrario fomenta la precariedad e impide el derecho legítimo de la ciudadanía a la cultura ya que solo unos pocos

museos y centros faraónicos culturales como consecuencia de los precios de los mismos

no solo entre ciudades sino también en lo que se refiere a los pueblos ya lo vimos en el pleno de la semana pasada con el decreto del gobierno que quiere limitar los espacios hosteleros que ofertan conciertos y expresiones culturales de forma gratuita porque esto es lo que ustedes están fomentando

un modelo cultural que genera parques temáticos de precariedad un modelo cultural del siglo veintiuno que ante los recortes presupuestarios y junto a la extensión del modelo empresarial

de otro tipo de negocio el derivado de la externalización de determinados servicios porque cada vez

que cubren estas necesidades mediante concurso eliminando el personal

o descartando desde el principio la posibilidad de contratarlo y a la vez que ciertas empresas

las trabajadoras que ellas subcontratan sufren las peores condiciones laborales que se puedan imaginar las directoras

fundaciones y administraciones que gestionan son perfectamente conscientes de que están alentando y dando cobijo al infra empleo

o les dan el visto bueno y este es el verdadero problema que debería abordar su departamento y usted

como consejero de cultura volviendo al caso de las trabajadoras

hasta el momento no se ha resuelto una situación de una precariedad laboral inaceptable en una infraestructura cultural bajo su

y se une a la lista de conflictos laborales y a la expansión y normalización de la precariedad en los espacios culturales en euskadi ante esta situación

qué actuaciones piensa realizar para mejorar las condiciones de empleo en la biblioteca y en otras infraestructuras y espacios culturales bajo su responsabilidad mila esker

presidente andrea legebiltzarkideok garcía andrea el proyecto conocido como es el programa de biblioteca de tabakalera una biblioteca que además del servicio de consulta de libros ofrece diferentes espacios servicios

es por tanto un proyecto de creación cultural especializado al igual que el propio centro en cultura contemporánea y ofrece una amplia gama de servicios a las personas que acuden a ubik sus servicios se iniciaron en dos mil dieciséis con la apertura del centro y son parte del proyecto cultural de tabakalera

en nombre del gobierno al departamento de cultura y política lingüística así es pero de ahí asegurar como hace usted en el texto de su interpelación

bajo mi responsabilidad yo creo que hay un trecho y permítame aclarar esta cuestión tabakalera es una sociedad anónima de carácter público participada por al ayuntamiento de donostia la diputación foral de gipuzkoa y el gobierno vasco y cuenta para su gobierno con un consejo de administración

y un órgano gestor profesional la dirección general que es quien asume la gestión y dirección del centro así como de sus personas y recursos

en representación de las instituciones fundadoras y por ello se han pasado en cada momento personas que representaban a las diferentes formaciones políticas que dirigían dichas instituciones por lo tanto por sus órganos de gobierno han pasado representantes de eh bildu y pnv en diferentes momentos y circunstancias

y los órganos de gobierno de tabakalera junto con su equipo de dirección fueron adoptando las medidas que en cada caso consideraron más apropiadas

en este contexto en el que se decidió que ubik contaría

perteneciente a la plantilla de tabakalera formado por cuatro personas asimismo se acordó que para la gestión de los servicios a los usuarios de ubik se procedería a la convocatoria de una concurso público mediante el que se contrataría una empresa especializada

así como del reclutamiento dirección y gestión del equipo humano necesario para prestarlos la organización actual de tabakalera y sus proyectos

información y mediación de la biblioteca de creación fue decidida por el consejo de administración de tabakalera el treinta de marzo de dos mil quince

y qué formaciones políticas tenían la mayoría en el consejo de administración de tabakalera la empresa ganadora para la gestión de los servicios complementarios de ubik fue la empresa sedena sedena es una empresa navarra que presta servicios de gestión en los ámbitos de la cultura el deporte

la organización de eventos y la prestación de servicios asistenciales para personas mayores y asociaciones

la gestión de espacios y actividades en la red de espacios socioculturales del ayuntamiento de pamplona de caja navarra los centros cívicos del ayuntamiento de tudela los servicios de la casa de cultura de zizur mayor o del palacio de la alfajería en zaragoza la conducción de actividades en caixa forum zaragoza el teatro centro cívico y espacio cultural de ansoain

la biblioteca infantil y apoyos en la biblioteca general de navarra y servicio auxiliares en el archivo general de navarra

en la prestación profesional de servicios culturales para organizaciones públicas y privadas en cinco comunidades autónomas y cuenta para ello

de los servicios correspondientes sedena tiene actualmente contratadas para la gestión de estos servicios de mediación de ubik en tabakalera a trece personas son profesionales que responden a un perfil de técnicos de atención información y mediación especializados en diversas actividades como videojuegos tecnología audiovisual sonido

fue la de efe pe dos diplomatura o grado universitario los trabajadores y trabajadoras que prestan estos servicios de mediación vinculados son por tanto personas empleadas de la empresa sedena y han desarrollado sus funciones en las condiciones acordadas con la empresa

por eso mismo ser modificadas en cualquier momento siempre que exista un acuerdo entre trabajadores y empresa y siempre que se haga mediante la negociación

o mediante acuerdos de otro tipo que las partes implicadas pudieran acordar las instituciones que participamos en tabakalera sabemos que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados de sedena que prestan sus servicios en ubik podría traer como consecuencia un cambio

y siempre hemos estado abiertos a analizar estas posibles consecuencias pero eso exige en primer lugar la conformidad de la empresa y por otro un acuerdo laboral entre sedena

que sea el resultado de una negociación y un acuerdo entre las partes en conflicto

un convenio laboral fruto de un acuerdo empresa empleados que obliga al contratante la directora general de tabakalera siempre se ha mostrado dispuesta a analizar esta revisión

por un acuerdo entre empresa y trabajadores y no entre las instituciones públicas vascas y las personas contratadas por sedena

la posición de la dirección general de tabakalera tabakalerako zuzendaritzak behin eta berriz adierazi du sedena eta bere enplegatuen arteko

señor zupiria no aspiro yo a ser consejera de ningún departamento de gobierno vasco pero si lo fuera no escurriría el bulto

de verdad se lo digo en ningún caso el máximo responsable cultural del país entiendo que puede mirar a otro lado cuando se está hablando de varios conflictos

espacios culturales que tienen responsabilidad directamente suya y más concretamente si encima estamos hablando de un caso el de tabakalera donde usted

creo que la responsabilidad es directísima no podemos o entiendo yo que no es responsable y que dado además su cargo

y a evitar hablar de las condiciones laborales de precariedad absoluta

el consejero de cultura si por ejemplo en otros casos me tocara interpelar a la consejera de seguridad le preguntaría por qué en el mismo caso de tabakalera la actuación de la ertzaintza ha sido desproporcionada

que entiendo que no se puede vulnerar pero en este caso estamos hablando de cultura y estamos hablando de modelo cultural estamos hablando de varios conflictos y en este caso es muy importante

yo lo tengo muy claro nosotras desde elkarrekin podemos llevamos tiempo denunciando que la privatización y la subcontratación impulsada por los partidos políticos que gobiernan nuestras instituciones

y un modelo que se trata como ya le he dicho antes de generar parece parques temáticos de precariedad en infraestructuras culturales del siglo veintiuno

tienen en común que es la administración pública la responsable de la gestión

en buenas condiciones sino tirar a la baja la licitación del servicio

y favoreciendo siempre los intereses de las empresas adjudicatarias y estos conflictos también tienen otra cosa en común el partido que actualmente está en el poder

estas trabajadoras solo pueden recurrir a la movilización y a la huelga para defender o reivindicar

estas huelgas se alargan en exceso por culpa de la nula voluntad negociadora de la administración de su partido o de usted mismo cuando es corresponsable

por eso le vuelvo a remitir la pregunta qué medidas va a tomar usted para solucionar un conflicto

en algo cronificado dentro del modelo cultural que usted como consejero de cultura entiendo que tiene para la cultura en euskadi eskerrik asko

señora garcía a

probablemente estemos viviendo situaciones parecidas en muchos lugares pero bueno yo asumo mi responsabilidad y acepto también la parte

y le he dicho que si existen unas condiciones para mejorar las condiciones de trabajo de esas personas y eso pasa por un acuerdo entre la empresa entre la empresa y los trabajadores a la que pertenecen o en la que están empleados vamos a hacer lo que esté en nuestras manos

y si hace falta y legalmente es posible modificar el contrato lo haremos

yo no soy quién puedo tener mi opinión propia pero pese a la responsabilidad que tengo creo que no soy quién para decir en qué condiciones

realizando la empresa en estos momentos y ante la que nadie en todos estos años ha dicho nada

de los parámetros del ocio la cultura y la animación y se corresponde con las condiciones que se están ofreciendo en otros lugares como zizur mayor

los gobiernos de estas ciudades cuentan con la participación de organizaciones afines a podemos o han sido

por eso me refería antes a que yo no miro a otro lado pero igual ninguno deberíamos hacerlo yo asumo mi parte de responsabilidad y le invito a usted a hacer lo mismo

su organización apoyándose en las condiciones que permite el nuevo acuerdo de la reforma laboral

nuestra responsabilidad y en los términos en los que está planteado hay un aspecto que me parece también muy importante y es que creo que

exigiendo reclamando otro marco otro convenio

y creo que tabakalera no debe aceptar ese nuevo convenio

están recogidas en el convenio que hace referencia al ocio y a la mediación cultural y creo que a eso deberíamos atenernos por lo tanto la invitación que yo haría a los trabajadores de sedena que prestan sus servicios en ubik es el de negociar con la empresa y alcanzar un acuerdo

ella no está acostumbrada a que se interesen por su trabajo pasa den igandean correo egunkariak hiru orrialdeko erreportajea eskaini zien

sirvientas doncellas criadas muchachas invisibles a como mucho diez euros la hora no cobro mucho pero la mayoría de las casas en las que he trabajado no son de gente rica

pero que necesitan que alguien cuide de sus viejitos dice una empleada del hogar la figura de la trabajadora del hogar viene a suplir en precario

inaccesible para las pensiones más ajustadas se crea la figura que paradoja esta de la doncella de los modestos escribe el periodista de el correo

y parece que aquí tampoco parece que este gobierno tampoco porque nos presentan planes contra la brecha salarial

y dónde están las trabajadoras del hogar en estos planes non dago bizitza sostengatzeko zaintza lanen ardura hartzen duten pertsonen balorazio soziala

hoy me gustaría sentarme y escuchar algo nuevo por su parte y no que les preocupa no que son una prioridad

porque mire vamos a repasar todas juntas la propuesta no de ley que fue aprobada por unanimidad porque vaya aquí lo que parece es que es un tema de eh bildu y no podemos decir que aquí la oposición al gobierno

en todo caso los cinco grupos que conformamos la cámara también los que sustentan al gobierno dos proposiciones no de ley tomadas por unanimidad en la que nosotras y elkarrekin podemos decidimos quedarnos fuera es decir que no está cumpliendo tampoco las peticiones hechas únicamente por los partidos que sustentan al gobierno

igual deberían de salir ellos y ellas a hablar y a preguntar en torno a ello pero bueno pongámonos a mirar el último acuerdo tomado vuelvo a repetir por unanimidad

e identificación de accidentes junto con osalan y en las preguntas que le hicimos al departamento de salud recibimos una respuesta que nos dejó

y se quedan tan tranquilos y no está la nueva consejera de salud para decirle que bueno espero que ellas nos de otro tipo de respuesta a estas preguntas porque usted sabe muy bien

lo hemos hablado y lo hemos compartido más de una vez y que se necesita la participación del departamento de salud para darle vuelta a esto los partes de baja que cumplimenta el personal médico de osakidetza tienen obligatoriamente que definir si es baja común o profesional y no ni hacen ningún paso para formar a los y las profesionales en ello bigarren puntua etxeko lanetan arriskuak prebenitzeko gida berritzeko eskatzen zitzaizuen

petición del diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras del hogar y aunque fuera un proceso separado también analizar

estuvieran excluidas de las ayudas para las excedencias ni uno

le dimos una prórroga hasta el último cuatrimestre del dos mil dieciocho y estamos a marzo de dos mil diecinueve dónde

el trabajo y dónde está nuestra decisión cuarto punto porque el problema no es que no tengamos diagnóstico el problema es que como le pedíamos en el punto cuarto que a partir de las observaciones de este diagnóstico este gobierno debía hacer un plan de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar aquí no hay nada no hay ninguna actuación y de mientras ustedes

a un diagnóstico para cuando venga y hagan el trabajo pertinente qué pretenden hacer un plan para los últimos meses de este gobierno quinto

pasemos al quinto el parlamento les instaba a que en tres meses una vez que tuvieran los resultados del diagnóstico

y con esto más de lo mismo siguen esperando y haciendo como hasta ahora cosa que se ha visto que no ha dado

la última vez que usted y yo hablamos lo hicimos justamente sobre cómo se aprovechaban las diferentes agencias de la situación de vulnerabilidad de muchas de las trabajadoras del hogar y del vacío legal que por parte de las instituciones parece que no hay intención de solventar para tener a mujeres

con jornadas laborales abusivas etcétera no vamos a volver a repetir lo que ustedes muy bien saben tenemos a mujeres esclavas en domicilios

tienen más de una denuncia sobre las prácticas abusivas de las agencias entre ellas estaba la que mencionamos en su momento empleadas del hogar

fue cerrada gracias a la movilización de las propias trabajadoras y no por el trabajo de su departamento y hay muchas otras que se pueden mencionar como por ejemplo

que si este tema no fuera tan serio nos reiríamos también del nombre

de buscar nombres para este tipo de agencias tiene encima de la mesa denuncias desde dos mil trece sobre esta agencia en concreto y no han hecho nunca nada

sin contrato en casas y en condiciones lamentables y me gustaría poder ponerles un video pero todavía no tenemos un parlamento dos punto cero que lo permita así que les recomiendo

no solo ella da su testimonio lo da también la persona que la contrataba el señor que estaba siendo atendido por ella

para que esta empresa no le hiciera lo mismo a otras y desde dos mil catorce no ha parado de hacerlo mujeres migrantes sin contrato en domicilios de los que no pueden salir y para poder hacerlo teodora tenía que pagar cien euros a una persona que supliera ese día suyo laboral por un sueldo de mil doscientos euros veinticuatro horas al día

y pasemos al sexto punto el último y no por ello el más importante a lanbide le pedíamos un proceso de empleo y formación y voy a leeros qué tenían o qué nos proponían como

realizar el proceso de elaboración de alimentos en su fases de compra organización efectuar un proceso de lavado planchado y cosido y realizar la limpieza de domicilios particulares
esto es lo que este gobierno pretende hacer con las trabajadoras del hogar y su situación eskerrik asko

el reconocimiento de las dificultades que estamos teniendo dentro del departamento de trabajo y justicia y en concreto dentro del organismo autónomo osalan para

aprobadas en esta cámara relacionadas con el diagnóstico de la situación del sector de personas empleadas del hogar y sus derechos laborales tenga la seguridad

se ha debido a la falta de interés por la problemática nos preocupan y nos preocupan mucho las razones de la demora voy a tratar de explicárselas y espero las comprenda no obstante puedo adelantarle que en un plazo muy breve podrán contar todos y todas ustedes con los documentos requeridos me va a permitir en mi respuesta que siga el mismo esquema que usted ha seguido de la moción

en este parlamento el pasado siete de junio de dos mil dieciocho en primer lugar respecto a la atención e identificación de accidentes laborales osalan tiene dos vías de acceso fundamentales para conocer los accidentes laborales que se producen en nuestra comunidad

y otra por medio de la aplicación denominada aplicación tramitación telemática de partes de accidentes y enfermedades profesionales

obliga a las entidades gestoras o colaboradoras de la seguridad social autorizadas a presentar en las veinticuatro horas siguientes a haberse producido

osalan controla diariamente las actualizaciones de esos archivos

real decreto ley dos mil veintiocho barra dos mil dieciocho de veintiocho de diciembre al incluir a los trabajadores y trabajadoras

profesionales nos permite conocer la siniestralidad de un sector importante que antes no se conocía

obligación del personal trabajador autónomo la cotización por contingencias profesionales por otro lado también cabe destacar la herramienta informática existente a disposición de todos los profesionales de atención primaria a través de la cual pueden comunicar a la unidad de salud laboral de osalan cualquier sospecha

de las dolencias manifestadas por los pacientes respecto a la guía básica de prevención de riesgos laborales para las personas trabajadoras del hogar le comunico señora etxebarrieta que

a todos y todas ustedes la guía que les aportaremos ha sido

osalan y a la misma se han añadido alegaciones presentadas por los sindicatos lab comisiones

a modo de resumen puedo decirle que esta guía se ha realizado a pesar de que la ley de prevención de riesgos laborales

a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar la elaboración de esta guía se basa en la convicción y constatación de que no es adecuado subestimar los riesgos que existen en el hogar de que existen riesgos potenciales

tipologías debido a la gran variedad de tareas desarrolladas por las personas de trabajadoras del servicio del hogar familiar se trata de un documento completo en el que se realiza

los riesgos se dividen en cuatro apartados riesgos asociados a las condiciones de seguridad desarrollándolos en ocho tipologías riesgos asociados al medio ambiente del trabajo donde se caracterizan cuatro riesgos

riesgos ergonómicos tratando especialmente los riesgos de trastornos ergonómicos y los riesgos psicosociales analizando los casos más relevantes como son las situaciones de estrés

o el maltrato y la violencia o acoso sexual este último apartado es fundamental y casi podríamos decir de incidencia especial en el servicio del hogar familiar el tercer punto de la moción aprobada por ustedes nos instaba nuevamente a remitir los dos estudios requeridos

las dificultades con las que nos hemos encontrado ha sido numerosas conscientes de esto encargamos al departamento de sociología y trabajo social de la universidad pública vasca que desarrollara el diagnóstico previsto de este trabajo tenemos ya algún avance y está prácticamente finalizado espero que tengamos el documento

el primer reto que han tenido que afrontar los investigadores tal y como lo reflejaban en su informe es la carencia

que nos puedan aproximar a la situación real estamos según definen los profesionales de la universidad del país vasco ante un fenómeno denominado realidad

con una parte sumergida cuyo abordaje sistemático resulta enormemente complicado las propias características de este sector

según un informe elaborado en dos mil dieciséis por encargo de la oit

al menos un treinta por ciento de las personas empleadas del hogar en españa trabajan sin estar afiliadas a la seguridad social un año después diversas informaciones corroboran el estudio pues según datos del ministerio de empleo había cuatrocientos veinticuatro mil trescientos noventa y cinco personas cotizando en el sistema especial de empleadas de hogar

mientras que la encuesta de población activa revelaba que en esa ocupación

de donde se deduce que solo el sesenta y ocho coma siete por ciento de estas personas se encontraban en situación regular en cuanto a la seguridad social la propia oit reconoce en una nota informativa sobre trabajo doméstico que las estadísticas oficiales tienden a subestimar el número de trabajadores domésticos

como un límite inferior a su extensión efectiva nos situamos pues ante un sector laboral cuantitativamente importante que en euskadi suponía en dos mil diecisiete una media

en los epígrafes correspondientes es de resaltar no obstante que estas

altamente feminizado el noventa y cinco por ciento de las personas empleadas son mujeres y con fuerte presencia de personas de origen inmigrante que supone según datos del observatorio vasco de inmigración la principal fuente de empleo un veintinueve coma tres por ciento para ese grupo de población respecto al segundo informe sobre los efectos que tendría la suspensión de los artículos catorce punto tres del decreto

treinta y uno barra dos mil quince que incluiremos en el que he dado cuenta anteriormente puedo decirle que la decisión se circunscribe a un ámbito competencial que no corresponde al departamento de trabajo y justicia porque las ayudas

en conclusión la situación de las personas empleadas del hogar es una cuestión que nos preocupa señora etxebarrieta más si cabe porque afecta fundamentalmente

los datos sobre el empleo sumergido en el sector la precariedad del mismo y otras circunstancias exigen no solo una toma de conciencia sino actuaciones pero quiero señalarle señora etxebarrieta que ni osalan ni el departamento de trabajo y justicia ni el mismo gobierno vasco

son necesarias medidas a diferentes niveles y coordinadas por nuestra parte trataremos con los departamentos del gobierno vasco que puedan aportar soluciones la elaboración del plan

por supuesto que estableceremos relación y trataremos de llegar a acuerdos con los representantes legales del sector

que actúan ilegalmente en la contratación de personas empleadas del hogar

en este caso en estos momentos están abiertas dos actuaciones de la inspección de trabajo

agencias de colocación las que actúan como intermediarias y no como contratantes le puedo asegurar que la inspección actuará como siempre con todo rigor y a lo largo de dos mil dieciocho y en lo que va de año se han llevado a cabo

en empleo doméstico empresas contratantes de personas empleadas del hogar que dan servicio a clientes

veinticinco actuaciones en relaciones laborales veintiuno actuaciones en seguridad y salud laboral y catorce en empleo

ocasión reitero mi llamamiento a que tanto personas individuales como sindicatos representativas de otras asociaciones denuncien los casos que pudieran tener un sesgo

acabo dejando patente que queremos apostar por la mejora de las condiciones y derechos laborales del colectivo de personas empleadas del hogar utilizando los medios con los que contamos que por sí solos
no van a constituir la panacea para corregir la situación eskerrik asko san josé

con las respuestas que me ha dado usted yo en su momento también le acepté y puse encima de la mesa que entendemos que diagnósticos de semejante calado necesiten sus tiempos de elaboración

por supuesto se podía y se debía alargar porque ese trabajo se hiciera en buenas condiciones lo necesario pero el problema es

agarrando a los diferentes puntos que vendrían después de ese diagnóstico y eso es lo que intentaba ponerle encima de la mesa en la interpelación

y tenemos que hablar y también ha dicho por ejemplo que con las actuaciones que hace osalan en torno a las agencias de colocación actuará como siempre el problema es que el como siempre no funciona en el caso de las trabajadoras del hogar tanto las

o a osalan el seguir haciéndolo como hasta ahora no hace que estas trabajadoras puedan

los accidentes laborales que han tenido porque es una situación muy específica muy especial que debería de tratarse de otra manera y eso es lo que ponemos en el primer punto

del propio osalan se hicieran de manera diferente con estas agencias porque se ha visto que hasta ahora el trabajo que se ha hecho no ha dado resultados porque

prácticas totalmente abusivas e ilegales en el segundo punto

y de que recibimos nosotros también gracias a la respuesta que nos dieron

pero me gustaría saber qué tipo de participación se ha llevado a cabo porque una cosa es recibir esos documentos pero luego cómo hacemos para integrarlos escogerlo integrarlo o vamos a hablar de cómo lo reformulamos porque una de las quejas que se hacía también por parte de las trabajadoras del hogar de bizkaia era

y para acabar estaría el tema del diagnóstico de verdad me he quedado un poco sorprendida con la respuesta que me ha dado sobre que las ayudas no corresponden a este departamento espero que esa no sea la respuesta que ponga dentro del diagnóstico porque si ha tardado
tanto tiempo hasta ahora para decirnos eso pues lo podría haber dicho antes eskerrik asko eskerrik asko

que sobre el asunto que nos ocupa hay todavía mucho que mejorar sin duda pero bueno por nuestra parte vamos a trabajar

que tenemos competencia para en primer lugar

que sea un punto de arranque para la mejora de las condiciones de trabajo de estas empleadas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales

la feminización de este colectivo que desde osalan en concreto apoyándonos en dos ejes fundamentales de la estrategia vasca de seguridad y salud laboral

dos mil veinte como son la cultura de la prevención y la generación del conocimiento en prevención de riesgos laborales vamos a impulsar acciones que tienen relación con el estudio que estamos

tiene dos vertientes una la interna dirigida a corregir disfunciones desde el punto de vista interno o de género en la organización misma a nivel interno

como una de las prioridades sectoriales dentro de la línea de promoción de la cultura de la prevención se encuentra la de incorporar la perspectiva de género en los programas

sobre los riesgos asociados al trabajo del hogar y como objetivo del citado plan para la igualdad

en este punto en el apartado destinado a realizar estudios específicos sobre determinados colectivos profesionales feminizados la primera acción se dirige al estudio sobre personas trabajadoras al servicio del hogar familiar y elaborar propuestas de actuación de los datos que he presentado antes

es necesario concienciar a las personas empleadoras y a veces también a las personas empleadas de la necesidad de mejorar los ratios de alta en la seguridad social

empleadas del hogar para mí este es un objetivo fundamental porque de ahí se derivarán el resto de medidas para una equiparación

sistemáticos de la inspección en este punto le digo que si bien vamos a mantener esa presión sobre la actuación de las agencias de empleo de las personas empleadas del hogar es más complicado la actuación directa sobre el domicilio sobre los empleadores individuales por las limitaciones legales que tienen

para hacer su labor en esos domicilios particulares por otra parte es preciso abordar por quien competa la equiparación de derechos en cuestión de protección social o de prestaciones tengo que decirle también y espero que usted lo reconozca que muchas de las medidas y

puesto que me refiero a abordar cambios legislativos que corresponden al congreso de los diputados en ese ámbito se han tomado ya medidas recientes por parte del gobierno

y del sector como es el incremento del salario mínimo interprofesional que afecta de una manera sustancial a las personas empleadas del hogar permítame para

el número ciento ochenta y nueve que trata sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos es necesario que dicho convenio se ratifique por el estado español dicho convenio reconoce las condiciones particulares en las que se efectúa el trabajo domestico por lo que son necesarias complementar las normas de ámbito general con las normas específicas para trabajadoras y trabajadores domésticas algunas de las medidas que se recogen en el convenio ya están en la legislación española pero es preciso avanzar

entre el personal trabajador doméstico y el personal trabajador en general estamos ante un problema complejo que no puede abordarse desde una respuesta simple requiere desde luego de un análisis multifocal y del reconocimiento

y de la implicación y propuestas positivas por parte de todos eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías consejera terminamos el pleno de hoy

sobre qué valoración tiene usted del acceso de los profesionales jurídicos a la plataforma es el instrumento electrónico por el cual se lleva a cabo todas las comunicaciones entre de una parte jueces magistrados fiscales

del sector que bien sean abogados bien sean procuradores bien sean graduados de justicia esta plataforma señora san josé es ilegal y usted lo sabe

el principio de igualdad recogido en el artículo siete del real decreto legislativo uno barra dos mil trece

señora consejera el texto refundido de la ley general que recoge los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social

tipo de discapacidad sensorial no pueden acceder a la plataforma porque no es accesible un error muy grave que tenía que haberse

diseño inicial de la plataforma no se hizo y han tenido que acudir

erkoreka el responsable de justicia acudieron personas afectadas por esta situación denunciando la imposibilidad de

lo consiguieron y usted señora san josé está discriminando con su actitud a personas especialmente vulnerables mujeres que sufren una discapacidad sensorial lo que yo le pregunto

señora san josé por qué mantiene esa actitud y hasta cuándo vamos a continuar con esta situación gracias eskerrik asko

sí que tengo que decir que cuando asumí la responsabilidad en este departamento se nos trasladó la problemática que había con este asunto y bueno desde el primer momento nos pusimos manos a la obra se realizó una auditoria por ilunion

que recoge un informe con una evaluación detallada de la accesibilidad de la aplicación cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a las personas usuarias y en particular aquellas con alguna discapacidad ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras actualmente se están llevando a cabo las tareas de mejora de la accesibilidad
derivadas del mencionado informe eskerrik asko

señora consejera en el año dos mil dieciséis una persona afectada tuvo que acudir al ararteko para poner en conocimiento
esa discriminación que estaba sufriendo por parte del departamento de justicia

ustedes me dice que han hecho una evaluación efectivamente la evaluación está hecha desde el mes de

agosto del año dos mil dieciocho está aceptada está aceptada en el presupuesto sabe lo que le contestan los funcionarios del departamento a esta persona cuando

sin que le tengan que señalar porque es una persona disminuida porque es la única que tiene que llevar todos los documentos en papel a los juzgados

y que es solamente una persona afectada eso nadie se lo dice por escrito nadie le da esa respuesta oficial el presupuesto está aceptado desde agosto

euros cuesta la solución informática pero es que han obligado a esta persona a que tenga que

ser quien ponga la solución el gobierno vasco no tiene equipos informáticos no tiene auditores informáticos para corregir

y ha tenido que ser ella la que les proponga la solución quienes auditen ellos pagándose quienes auditen

les pongan la solución el presupuesto está aprobado desde agosto del año pasado

euros y esta persona está siendo discriminada señoría esto es una conculcación del real decreto ley al que me he referido es una falta muy grave prevista en el noventa y cinco

de ese texto legislativo está castigado con importantes sanciones económicas a quien cometa faltas graves porque se vulnera el derecho

de una persona que tiene una discapacidad sensorial me parece muy duro llamarle a una persona vulnerable porque le conozco desde hace más de veinte años y es una aguerrida abogada y yo no le veo especialmente vulnerable pero usted está haciendo con su actitud
no solo una discriminación hacia una mujer sino además una ilegalidad eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

ruiz de arbulo ya le he explicado en mi primera intervención que desde luego con esa auditoría realizada se están realizando las adaptaciones necesarias y por supuesto que desde luego esto no tiene nada que ver ni con presupuesto ni vamos simplemente que es una aplicación en continua mejora y desde luego adaptación legal a las condiciones que tiene que reunir esa aplicación

esa persona pueda desempeñar su trabajo yo le digo desde luego que sí que se está haciendo

teniendo en cuenta esta necesidad pero no solamente para esta persona que tiene esa discapacidad en este sentido sino para todas las personas que en un momento determinado puedan tener esa discapacidad cualquier colectivo que tenga que converger en esta aplicación y bueno pues estamos mirando las formas

abordar este asunto que ya le digo que ni es un tema presupuestario sino que es un tema que exige